efectivamente el lehendakari trasladó el pasado día diecinueve de octubre a la vicepresidenta primera

en respuesta a la petición por escrito que la propia ministra de economía envió a todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas a día de hoy dos meses después el lehendakari no ha recibido respuesta alguna lo cual si le soy sincero

pero la planificación y la programación de inversiones es imprescindible tanto para las instituciones públicas como para el sector privado

son tres proyectos definidos con visión de país interinstitucionales que integran proyectos recogidos en euskadi next coherentes

con el plan de recuperación español ejecutables en los plazos marcados por europa y transformadores de la economía vasca

porque las instituciones vascas habremos de aportar los recursos propios

que en función de lo que se reciba sean necesarios quiero dejar constancia de que estos fondos son fondos europeos es decir que aunque cada estado miembro sea el órgano ejecutor ante europa esto no debiera implicar que sea el órgano decisor de hecho el propio reglamento de los fondos establece que los gobiernos regionales habremos de ser consultados

llevo diciendo hace más de un año que se estaban dando elementos que distorsionaban la buena utilización de estos recursos como por ejemplo estrechar los plazos de ejecución a dos mil veintitrés cuando europa permite ejecutar hasta dos mil veintiséis esta misma semana hemos

el perte de energías renovables hidrógeno verde y almacenamiento que dicho sea de paso para euskadi tiene una enorme relevancia con un plazo de ejecución hasta el dos mil veintiséis rectificar es de sabios y en esto nos estamos jugando demasiado todos

la gestión estatal de los fondos europeos transferidos a las comunidades autónomas ha estado sembrada de inseguridad jurídica y de imposición hemos trasladado este sentir

y lo seguiremos haciendo de cara a mostrarles las disfunciones que se están dando en este arrancar esperamos que nuestras aportaciones siempre con carácter constructivo

donde entendemos que euskadi tiene más margen de maniobra es ahí donde nuestros proyectos

y es ahí donde la agilidad y flexibilidad han de ser protagonistas con el foco puesto en la transformación económica de nuestra economía por lo tanto señora berrojalbiz verá usted que este gobierno no se encuentra del todo satisfecho pero sí le aseguro que seguiremos trabajando de forma intensa desde todos los departamentos e instituciones de euskadi para sumar a nuestros propios recursos la mayor cantidad de los recursos procedentes de europa eskerrik asko

nuestra prioridad ahora es hacer frente a la covid hemeretzi

nuevos contagios trescientos seis personas ingresadas en planta

esa es la realidad y usted la conoce y usted conoce que eso tiene que tener consecuencias

pasa al tercer escenario de los cinco previstos en el plan de contingencia de las uci pero una cosa sí le quiero dejar clara

no dejará a nadie atrás a nadie la prioridad como ve es la covid pero toda persona que necesite asistencia sanitaria en euskadi la tendrá

el mes pasado el consejo de administración de lanbide donde tienen asiento todos los agentes sociales aprobó el proyecto de lanbide

se trata de un paso más en el profundo proceso de transformación de lanbide que afecta desde sus estructuras sus oficinas pasando por más de una veintena de proyectos

la empleabilidad de las personas que tienen mayores dificultades como los jóvenes las mujeres mayores de cuarenta y cinco años o personas con discapacidad

es emplear la inteligencia artificial para conectar los datos de las necesidades de las personas trabajadores con las ofertas que tienen los

se trata de un proyecto ambicioso que es un elemento tractor de la propia estrategia vasca de empleo dos mil treinta que este parlamento avaló con una amplísima mayoría en el mes de mayo y en la que todos participamos haciendo nuestras aportaciones como un proceso de pacto de país por el empleo por un empleo de calidad inclusivo

uno de los compromisos para este año que viene acabando era la creación de una oficina virtual que se suma a las cuarenta y dos oficinas físicas con las que ya cuenta el servicio público de empleo y ayer se hizo una presentación pública nueva herramienta y aprovechando esto los socialistas entendemos que es importante que este parlamento conozca cómo se va a concretar este proyecto desde la convicción

sino la transformación de nuestras políticas y la utilización de las políticas activas de empleo como una palanca en este proceso de transformación para impedir que se nos escape

en ese sentido señora vicelehendakari es por lo que le formulamos la pregunta de cómo se va a concretar la oficina virtual de lanbide eskerrik asko

dos mil veintidós vamos a seguir manteniendo las cuarenta y dos oficinas físicas que tiene lanbide que le acercan al territorio y a las personas

virtual con una nueva experiencia centrada en las personas y también en las empresas y esa oficina

virtual que inicia su andadura en enero del año dos mil veintidós se va a ir construyendo de la propia experiencia que tengamos con esas personas usuarias

es la primera experiencia de este tipo en las administraciones públicas vascas es verdad que hay alguna experiencia similar en otras dos comunidades autónomas pero lo importante de esta oficina virtual y lo que sí quería comunicar a este parlamento es que no se trata de una relación telemática que eso ya existe en la administración pública y por supuesto en lanbide a través de lanbidenet

esta oficina lo que ambiciona es tener un carácter integral es decir que tú en la oficina virtual puedas llegar a hacer todas las tramitaciones y la oferta de servicios que

física por lo tanto sería ahora mismo la oferta va a iniciar de una manera limitada prudente con la orientación y luego también integrando todo lo que está en lanbidenet a través de la

para nosotros el centro como decía son las personas y

este nuevo canal en definitiva es un nuevo canal para una nueva era somos conscientes

en nuestras vidas cotidianas y por lo tanto este es un nuevo canal como les decía para una nueva era donde la tecnología es un medio pero no es un fin en sí mismo y donde sabemos y somos conscientes de la importancia que va a tener en los próximos años la formación

siga avanzando y ofreciendo nuevos servicios a una ciudadanía vasca de un país que quiere seguir siendo competitivo y donde las personas y el capital humano es clave para el éxito

han pasado un año y nueve meses desde que se decretó el primer estado de alarma y podemos entender que desde luego ante una situación que es imprevisible que es desconocida y en la que concurren además elementos que son incontrolables por parte que no corresponde controlar a este gobierno entendemos que sea difícil hacer frente a esta gestión

lo comprendemos sin embargo es un poco ya más difícil de comprender y de entender que

de la pandemia vuelva a pillar al gobierno con el pie cambiado y que se nos traslade esta sensación de improvisación en las medidas y que tengamos que leer noticias como osakidetza suspende las consultas de seguimiento no urgentes

por el aumento de la presión la atención primaria sobresaturada en euskadi hospitales vascos piden voluntarios para la uci cuya ocupación ha subido un treinta por ciento en una semana

bolondresak ari direla eskatzen bolondresak lan egiteko uzietan un año y nueve meses

sabemos perfectamente que cuando sube la incidencia aumentan los ingresos hospitalarios incluso aunque sean en menor medida

a la vacunación no tener el sistema sanitario debidamente preparado

ya no es una eventualidad creemos que no es de recibo como tampoco es de recibo tachar de irreal la propuesta que hacíamos

de refuerzo que se había decidido prescindir de ellos porque parecía que la pandemia remitía por eso yo sí tengo que pedirle quiero pedirle lehendakari que refuerce

la suya propia como gobierno vasco rastreos ventilación efectiva pedagogía previsión y desde luego que cuide

que estamos ante algo desconocido e imprevisible debería llevar también a reconocer también honestamente que el pie cambiado sí podemos o puede pillarnos con el pie cambiado pero está pillando con el pie cambiado a todo el mundo

hemos declarado la emergencia sanitaria y tenemos una estrategia clara compromiso y corresponsabilidad individual y colectiva

en relación a lo que es nuestra acción como gobierno primero vacunación extender la tercera dosis y proceder a la vacunación de los menores de doce años con la mayor celeridad posible

hemos incrementado el número de puntos para citas diagnósticas y reforzado los equipos para la realización de test hemos duplicado los equipos de la red de rastreo señora gorrotxategi tercero extender el certificado covid a todos los ámbitos en sea posible y útil esta es una estrategia de refuerzo de la

cuarto seguir insistiendo en el consejo interterritorial en la propuesta de refuerzo de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores o la limitación de aforo en eventos deportivos así como una legislación garantista en todo caso apelamos al compromiso voluntario de uso de mascarilla siempre tanto en interior como en exterior quinto

reiteramos el llamamiento a evitar situaciones de riesgo como celebraciones entre personas de diferentes núcleos familiares instamos a que las celebraciones familiares se reduzcan y limiten

estas son las medidas que estamos adoptando cada semana comparecemos ante este parlamento

está en su mano proponer nuevas medidas concretas hágalo tan solo le pido

las circunstancias propias de cada momento todo tipo de contextos geográficos económicos sociales y emocionales eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

de sesiones y despediremos dos mil veintiuno todavía con muchos interrogantes abiertos como hemos visto esta misma semana el peor la situación sanitaria a pesar de su

pero todos sabemos que hemos alcanzado esta semana la tasa de contagio del coronavirus más alta en toda la pandemia y volvemos a encabezar las peores cifras de toda españa estamos en récord de incidencia y nos preguntamos por qué por qué vivimos esta situación una vez tras otra

el coronavirus perjudica de nuevo la atención a otras patologías y en lo económico

sobre múltiples sectores comenzando por la hostelería el comercio o el turismo

es urgente poner en marcha verdaderos mecanismos de apoyo a esos sectores nuevamente golpeados medidas fondos ayudas que verdaderamente lleguen

sin embargo para dos mil veintidós los partidos que le apoyan y apoyarán sus presupuestos respaldarán el presupuesto del señor sánchez es decir

la presión fiscal y que reman en contra de la recuperación por más que usted defienda que es el mejor acuerdo posible

que dentro de pocos días aprobarán para euskadi aprobaremos

un presupuesto que representa una pérdida de oportunidades en la salida de la crisis y la creación de empleo es decir unas cuentas contrarias al interés de los vascos

de ronda por navarra tejiendo proyectos expansionistas o repensando el futuro de españa con aragonés o sea buscando en cataluña acercar posiciones entre su nuevo estatus y el referéndum independentista defendido por la generalitat

por todo ello le pregunto lehendakari cómo valora la situación de euskadi ante el fin del dos mil veintiuno eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz en esto de la ronda mire le anuncio que el próximo día veintinueve

para firmar junto con él un protocolo general de colaboración entre euskadi y castilla león creo que la junta general de castilla y león está presidida por el partido popular muy bien dena den

y de lo que me alegro lehendakari que hable con el señor mañueco se reúna con el señor mañueco presidente de la junta de castilla y león y además le invito

a ampliar sus rondas viajeras a buscar referencias de eficacia de prosperidad de recuperación haga una ronda viajera por andalucía

porque seguro que va a aportar más esas reuniones al futuro de los vascos que su puestas en común con el radicalismo catalán y con el señor aragonés eso estoy convencido

requiere rectificaciones lehendakari yo sé que para ustedes es más importante

que mejorar la asistencia primaria que está llena de quejas y que necesita inversión o yo sé que para usted es más importante abrir esas pseudoembajadas en japón y corea que dar más ayuda a hosteleros a comerciantes

y yo creo que se necesita ese dinero que se quede aquí en euskadi que no se vaya para farolillos asiáticos señor

que piense en el interés de los vascos como le decía

para hacer cuestiones y para cambiar cosas algo habrá que cambiar también en la sanidad como le decía anteriormente oiga no hay rastreadores suficientes aunque usted diga que hay más rastreadores la señora sagardui hoy ha dicho que estamos en el tercer nivel de cinco y la pregunta que nos hacemos y por qué

en el nivel tres de cinco por qué lehendakari por lo tanto

está fallando clarísimamente y tienen ustedes que reconocerlo por lo tanto yo creo que ustedes tienen que mejorar

en esta ronda que usted me invita a que haga al margen de que pueda tener la consideración o la connotación de expansionismo por parte de euskadi

es por algo sí ha mencionado en todo caso no tengo ningún problema como tampoco lo tengo en compartir con galicia señor iturgaiz con galicia lo que es el eje del arco atlántico del cual también soy presidente señor iturgaiz en ningún momento he ocultado las dificultades son muchos los padecimientos personales familiares y sociales los conozco lo comprendo y lo sigo de primera mano

y que nos estamos guiando por el análisis de la información diaria y las recomendaciones científicas y sanitarias buscando un equilibrio que preservando la salud pública

es importante para el bienestar personal y colectivo los problemas son inmensos pero la situación económica por ejemplo se recupera y la sociedad lo reconoce este año vamos a crecer un cinco coma seis por ciento y trece mil cuatrocientos personas encontrarán un empleo el año que viene creceremos el seis coma siete por ciento

la tasa de paro será del nueve coma dos por ciento que era el objetivo para toda la legislatura por lo tanto euskadi crece crea empleo

es de estabilidad el gobierno rinde cuentas públicas y cumple su programa hay diálogo entre los partidos políticos y acuerdos institucionales no hay rodillo por ejemplo

casi la mitad de los acuerdos en esta cámara se han logrado con la participación de algún partido de la oposición también el suyo señor iturgaiz la corrupción o la crispación política no se encuentra entre las preocupaciones de la sociedad vasca

contamos con los medios los recursos las y los profesionales

le animo a compartir una actitud y un mensaje que traslade esperanza a la ciudadanía vasca hemos superado las cinco las anteriores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

hace poco más de un mes anunció en este mismo escenario que hoy mismo procedería a la entrega de los primeros cuadernos de la memoria y reconocimiento a familias de víctimas de crímenes de eta aún sin resolver de los que se desconoce la autoría intelectual material o ambas usted mismo nos explicó que es algo similar a un dossier con imágenes y textos

según declaraciones suyas y de otras personas ligadas a su gobierno con esta iniciativa pretenden el reconocimiento individualizado de aquellas víctimas que merecieron

un reconocimiento ético y humano de la injusticia que padecieron no voy a criticar el gesto obviamente es bienvenido todo lo que se haga para minimizar el impacto de no saber el nombre de los asesinos

pero opino que se queda corto porque el duelo depende de forma muy notable del saber

por ello señor lehendakari le pregunto cuáles son los pasos que prevé dar el gobierno vasco para el esclarecimiento de todos los crímenes de eta pendientes de resolución

sabemos también y usted lo debería saber que por cuestiones de legalidad no está en nuestra mano ofrecer una justicia material a las víctimas las razones son diversas además de la separación de poderes según el ordenamiento jurídico una importante es la prescripción de la responsabilidad penal

en todo caso desde el punto de vista del derecho a la verdad tenemos el compromiso y también la responsabilidad de posibilitar a las víctimas toda la información disponible
así como un reconocimiento personal y humano ante la injusticia padecida así lo estamos haciendo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

señor lehendakari compromisos de última hora harán imposible que esta tarde yo esté presente en bilbao en el acto de entrega de los primeros cuadernos de memoria y reconocimiento y le prometo que me da mucha pena
me habría gustado mucho participar y representar a vox por responsabilidad y respeto a las víctimas del terrorismo

pero también percibo un cierto aroma propagandístico en el acto organizado por hoy en la propia iniciativa

no imagino que estos cuadernos vayan a mitigar el dolor de lo que pudo ser una mala gestión de sus casos concretos el derivado de perder la esperanza de que los culpables paguen por el daño causado

de esos casos sin resolver no cejar en ese empeño y además le voy a refrescar la memoria hay un cierto baile de cifras el propio ministerio de interior no tiene claro si eta asesinó

afín a la banda criminal de cualquier forma y este dato es escandaloso el memorial de víctimas del terrorismo sostiene que el cuarenta por ciento de estos casos siguen sin estar resueltos los culpables los verdugos ni han sido juzgados ni condenados la cifra oscila entre trescientos once y trescientos setenta y ocho crímenes sin resolver en cualquier caso

y detengámonos un momento en las causas para que la situación sea esta la situación de terror que se vivía en el país vasco en los primeros años de la democracia el aislamiento y la presión a la que fueron sometidos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado mal funcionamiento de órganos judiciales

no investigados escasa colaboración internacional fallecimiento de etarras no juzgados problemas para convertir información en pruebas como usted sabrá el diez de noviembre tuve estrecho contacto con víctimas de eta algunas de ellas doblemente victimizadas porque ni saben ni creen que llegaran a saber quién dio la orden

porque les resulta muy difícil asumir que no tendrán la certeza de que los asesinos pagan por sus crímenes en la cárcel

partiendo de la necesidad humana de poner cara a los culpables de su dolor

la cara de esos culpables sus palabras reconociendo a los presos de eta como los suyos

su insistente victimización de los verdugos le convierten en culpable y qué decir del señor david pla a quien conocimos con capucha en aquella mesa engalanada con la serpiente y el hacha etarra

menciona precisamente al ministerio de interior ministerio de justicia colaboración internacional cuestiones que no son cuestión de este gobierno o competencia de este gobierno

mire nuestro compromiso con las víctimas y con el derecho a la verdad de las víctimas no comienza con esta iniciativa ha estado presente siempre en nuestra trayectoria personal e institucional y política

hace casi ocho años el cuatro de marzo de dos mil catorce el gobierno vasco encargó un informe sobre atentados terroristas con resultado de muerte no esclarecidos cometidos desde mil novecientos sesenta

hemos elaborado numerosos informes informe de clarificación del pasado así

informe sobre la injusticia padecida por el colectivo de ertzainas y sus familias a consecuencia de la amenaza de eta dos la extorsión y la violencia de eta contra el mundo empresarial tres

cuatro también estamos desarrollando el proyecto cuadernos de memoria y reconocimiento un documento monográfico para la familia de cada víctima del terrorismo cuyo asesinato no haya obtenido un esclarecimiento suficiente

se ha basado en un trabajo de recopilación de información que de acuerdo con el gobierno vasco ha realizado la asociación de víctimas del terrorismo señora martínez cada cuaderno lleva anexa una acreditación oficial del gobierno vasco en la que se recoge expresamente la injusticia y el sinsentido del sufrimiento

hasta este momento hemos elaborado ochenta y seis cuadernos que corresponden al período comprendido entre mil novecientos sesenta y mil novecientos setenta y nueve

en un solemne y emotivo acto institucional expresión de nuestro homenaje y reconocimiento ético y humano ante la injusticia que padecieron este proyecto

exclusiva del gobierno vasco va a continuar para seguir proclamando que la vulneración del derecho a la vida de cada víctima asesinada por eta fue una injusticia
que nunca debió producirse eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

salatu izan duen anomalia bat da el propio pnv realizó esta misma petición en el dos mil diez y consideraba que las cooperativas deben estar presentes

a la hora de diseñar las políticas de empleo denunciaban entonces que era cuestión de voluntad política que las cooperativas podrían incluirse en lanbide si había una voluntad política

konpromiso bat anomalia hori zuzentzeko eta lo que le pedimos es esa anomalía y un compromiso para que se levante el veto que ahora las cooperativas tienen para formar parte del consejo de administración de lanbide

zein izan zen aldarrikapena nuestra voluntad señora kortajarena es que el movimiento cooperativo esté presente

y en los organismos de carácter socioeconómico con que contamos en euskadi y trabajamos por la asunción de naturalezas jurídicas diferenciadas en esa participación

valoramos muy positivamente la labor de todos los agentes sociales que se implican también en los foros de diálogo social no solamente la economía social

pregunta para que apoye también explícitamente la participación de todos los agentes económicos y sociales no solo en lanbide sino en todos los foros existentes

compartiendo los mismos compromisos son la manera más eficaz práctica y productiva de influir en las políticas públicas de empleo las políticas de formación las políticas de salud
o las políticas de seguridad laboral que también usted ha mencionado eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

zurea da hitza muchas gracias presidenta buenos días
lehendakari consejeros consejeras señorías bien dos cuestiones podríamos pedirle al señor vicelehendakari al consejero de seguridad como responsable

especiales de emergencias en relación cuestiones en relación con lo ocurrido en las últimas semanas en la gestión del riesgo de las inundaciones por un lado yo creo que es bueno que nos haga una evaluación de lo ocurrido un balance de daños y por otro lado pues algo lógico también en relación con qué medidas

de las graves inundaciones acaecidas toda la sociedad todos nosotros hemos podido seguir por los medios de comunicación y algunos viéndolo físicamente lo que al pasar de los días

se convirtió en una situación problemática muy problemática también

sobre si sigue habiendo riesgo de que vuelva a producirse esa situación y cómo está funcionando en este momento

disponen de un plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones en la comunidad autónoma vasca este

pues donde se hace un análisis de la gestión del riesgo de inundación o donde se establecen los sistemas de previsión del riesgo de inundaciones o

después de los desembalses de agua o los planes de actuación municipal y foral

capacidades y la actividad del gobierno vasco o de ura en relación con

conocer también esa gestión de ura de la agencia vasca del agua hemos visto también que algunas localidades algunos

pueblos o barrios de vitoria han criticado también determinadas gestiones realizadas

a las inundaciones producidas las intensas lluvias constantes durante muchos días las nevadas

que se han producido estas semanas anteriores han causado graves inundaciones y daños

históricos en los tres territorios de la comunidad autónoma del país vasco se han visto afectadas lo hemos visto permanentemente se han visto afectadas explotaciones agrícolas ganaderas carreteras y otras infraestructuras de comunicación

empresas comercios así como viviendas con un perjuicio grave para decenas de miles de personas hemos visto

imposibilidad de atender como se debiera a las personas hemos visto destrozos hemos visto contaminación de espacios cortes de electricidad bueno efectivamente todo eso lo hemos

de analizar es el momento del balance de los daños de la evaluación de la catástrofe de las medidas a adoptar por las administraciones yo creo que es muy importante

supongo de la colaboración institucional porque hay cosas que quedan pendientes hemos visto las inundaciones han puesto de manifiesto que hay obras que hay que abordar y que no se han abordado

hay ciertos retrasos por eso mismo la colaboración interinstitucional con entidades públicas afectadas es importante y eso es lo que necesitamos que el gobierno en este momento valore y qué se está haciendo y sobre todo

en algunas cuestiones es una asignatura pendiente parece que se habían identificado algunos problemas pero bueno en definitiva cómo va cómo se está cumpliendo o cómo se ha cumplido o cómo se valora el plan especial de emergencias en relación

unos impresionantes desembalses que lo hemos visto pocas horas antes de las inundaciones

si había riesgo había previsión se podía haber desembalsado

esos elementos tendrán que decirlo pero bueno son traer un poco el análisis porque

esas cuestiones dicen se podía haber evitado o no son cuestiones que están en la calle y nosotros nos hacemos eco lógicamente para saber y conocer

esa valoración de los daños y las medidas que se van a adoptar a través de esta interpelación leíamos

consecuencias de inundaciones en dieciocho años o y en gipuzkoa decía en diez años lo decía la prensa el otro día en el análisis de este tema o sea que quiero decir que el riesgo está ahí ha estado está

yo creo que habrá que tomar medidas o habrá que aprender o tomar lecciones en relación con cómo seguir

en esta situación también hemos visto la preocupación del sector agrícola en relación con lo que ha pasado con la tierra que se lleva el agua o los taludes de los ríos con la posibilidad de la vuelta de esa situación

algunos de los cultivos algunas de las cuestiones bueno hay muchas cuestiones que se ponen sobre la mesa y como decía antes que afectan a muchos ámbitos

comercio a la industria etcétera etcétera por eso

en relación con las medidas a adoptar para paliar las consecuencias de las graves inundaciones ocurridas en el país vasco en diciembre está bien claro que también

saber cómo ayuda cómo gestiona el gobierno vasco también lo que tiene que ver con los seguros con las posibilidades de ayudar

en relación con las compensaciones y con los seguros y la tramitación y saber en qué momento estamos en esta cuestión muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

leí el texto escrito en su interpelación le confieso que me vino a la mente aquella

de la sabiduría popular que recomienda no empezar el credo

poncio pilato una reflexión insisto que usted por la

que yo puede comprender perfectamente dudo que haya generaciones posteriores que entiendan el alcance y significado porque

puede extraerse una conclusión en relación con esta reflexión veo que

esa reflexión que me provocó la lectura escrita de su interpelación

notablemente en su intervención de ahora porque he visto que efectivamente usted

de que las reparaciones la labor de recuperación que es preciso abordar a partir del momento en el que

la semana anterior solo puede analizarse de manera cabal y coherente en el contexto digamos del sistema vasco de gestión de emergencias y protección civil

integral de conjunto desde hace ya más de diez años

en el sistema de seguridad probablemente esta integración es anterior pero una ley aprobada por este parlamento el año dos mil doce la ley de ordenación del sistema de seguridad del país vasco

que no la circunscribe no la reduce al ámbito solamente de la policía y de la seguridad ciudadana sino que considera que

que abarca de alguna manera todas aquellas medidas públicas que han de adoptarse para afrontar determinados riesgos y amenazas que afectan a la convivencia y al bienestar de la ciudadanía lo cual

esto tiene sus consecuencias importantísimas también en el ámbito de la gestión de las emergencias y de la protección civil porque significa que

comparte una serie de principios con el sistema de seguridad que son fundamentales son

entre otros los principios de planificación de prevención de intervención de recuperación y también de evaluación son principios que comparten

en el caso vasco en el plan general de seguridad pública de euskadi que se aprobó este mismo año por el gobierno vasco hasta el año dos mil veinticinco y que yo mismo defendí en la

de la cámara hace ya varios meses donde se contemplan expresamente entre las amenazas y los riesgos que afectan o que se ciernen sobre hacia la ciudadanía vasca los específicamente relacionados con los fenómenos naturales

adversos muchos de ellos relacionados con el cambio climático

comprobar no solamente en euskadi sino también en otros ámbitos territoriales estos

que son pilares fundamentales significan que en el ámbito de la gestión de las emergencias y de la protección civil hay una actividad planificadora intensísima de hecho la ley

una amplia tipología de planes que inciden en el ámbito de la gestión de emergencias y de la protección civil hay planes territoriales y hay planes especiales

y los planes especiales son los que tienen que ver con problemáticas específicas y que requieren metodologías singulares y propias para

en euskadi lógicamente tenemos un plan especial usted lo ha traído aquí a la mesa un plan especial para el riesgo de inundaciones no podía ser de otra manera en un país como el nuestro

a lo largo del tiempo y todos a lo largo de nuestra vida hemos podido conocer episodios de esa naturaleza de mayor o menor gravedad

se subrayan otros riesgos y amenazas pero el nuestro por ejemplo no es un país volcánico no es un país que acuse por lo menos movimientos sísmicos o terremotos pero sí es un país de precipitaciones y riadas y por eso tenemos un plan específico un plan especial para esa materia que es del año

la versión del año dos mil quince pero le puedo asegurar que se actualiza rigurosísimamente con mucha frecuencia este mismo año

de consejo de gobierno para actualizar el plan y además

actualiza sino que se adapta a los requerimientos de la unión europea que hace tiempo ya que viene requiriendo a los poderes públicos del marco europeo la elaboración de planes específicos

hidrológicas hoy por tanto yo creo que ese es el primer punto a destacar qué se puede decir en relación con

aquí en euskadi yo creo que hay dos claves fundamentales primero primero en euskadi el plan especial

de una idea organizativa en la que los servicios de prevención los servicios

no son servicios concebidos solamente para anticipar el tiempo de cara a que la ciudadanía organice su ocio o su tiempo libre son unos servicios meteorológicos al servicio

para captar los datos para reunir toda la información y ponerla al servicio del

una concepción importantísima que marca diferencia en relación con otros ámbitos territoriales en los que esa utilidad

no sirven no se utilizan no se optimizan y aprovechan por el sistema de emergencias y protección civil aquí no aquí

la coordinación que en todo momento se establece sobre todo con la agencia de gestión del agua de ura y con el resto de las entidades públicas y privadas que se ocupan de la gestión de en fin de la gestión del agua y de la gestión

el plan especial descansa por tanto sobre estos dos elementos que garantizan aseguran de alguna manera su buen funcionamiento efectivamente en el episodio

entre el veinticuatro de noviembre y el doce de diciembre hemos tenido dos periodos particularmente intensos de precipitaciones que han generado también algunas riadas

sendas activaciones del plan especial hemos activado el plan especial en dos ocasiones durante las últimas cuatro semanas en el primer caso

en el segundo hemos llegado a la fase de emergencia situación dos lo cual significa un nivel de gravedad un poco superior

consejo asesor del plan especial constituido en mesa de crisis ha funcionado

con la aportación de todo tipo de instituciones y actores que operan en este ámbito la valoración que todas ellas

los servicios meteorológicos han funcionado han hecho sus predicciones las predicciones se han puesto al servicio del sistema

ura hiciera también sus previsiones de manera que se pudiera localizar con bastante precisión en qué lugares podían producirse problemas de inundaciones como consecuencia de la ubicación geográfica que los servicios meteorológicos hacían

en las próximas horas y el sistema de avisos de alertas a la ciudadanía

a los servicios municipales a todos los niveles ha funcionado

en relación con esta cuestión pero la valoración esencialmente ha sido positiva y se ha puesto en valor entre otras cosas también no solamente

la cantidad de obras de infraestructura que han venido realizándose durante los últimos años

por poderes autonómicos por ura por

por las diputaciones en el ámbito que les corresponde estableciendo límites que contengan las aguas en zonas en las que habitualmente se desbordan y

la evaluación de daños efectivamente se está haciendo ahora en este momento y empezamos la fase de recuperación una fase de recuperación en la que

que la responsabilidad y la competencia del departamento de seguridad en principio es menor

es el responsable de la gestión de la emergencia no es el único responsable de la gestión de los daños y de la fase concretamente de recuperación
ahí tenemos una larga trayectoria en el gobierno de los últimos años que es la que en principio se va a aplicar aquí se lo explico en la segunda parte eskerrik asko

gracias presidenta gracias señor erkoreka yo

sé y la verdad es que la de poncio pilato es la parte que menos me gusta porque es un personaje que me cae muy mal o sea que yo sé muy bien que el credo empieza por el creo en dios padre y por eso he hecho la interpelación precisamente

más que el hecho de preocuparme como grupo parlamentario de la oposición por algo que ha sido grave y que nos ha afectado a decenas de miles de vascos

sí que quiero seguir escuchándole en los cinco minutos que todavía le quedan porque yo creo que hay cuestiones pendientes efectivamente yo le formulo

a otros consejeros en el ámbito de la agricultura o en el ámbito

esta cuestión y usted es vicelehendakari y lógicamente en ese sentido tendrá toda la información coordinada del gobierno y por eso yo creo que todavía quedan cuestiones

dispone el gobierno vasco también le he hecho una pregunta en relación con en este momento tendrán que funcionar los seguros y que si hay alguna especie de apoyo

muchos buscan la asistencia de las administraciones del gobierno vasco o de otras

y cómo se les ayuda y también en relación con el con el plan con el plan de emergencias es interesante que es una cuestión que está en permanente

y si es necesario revisar o reforzar o reformar el plan especial de emergencias ante el riesgo de las inundaciones en la comunidad autónoma hemos visto que por lo que ha sucedido porque bien efectivamente no tenemos volcanes o

que es muy fácil que se corten vías de comunicación y eso hay que evitarlo eso las administraciones tienen que evitarlo lógicamente con una

estoy seguro además que ustedes como gobierno y como gestores

tienen sugerencias a las administraciones locales o forales tienen porque habrán visto

habrá hay que asegurar el hecho de evitar estos incidentes también por su parte ustedes habrán podido contemplar que hay algunas actuaciones que no han funcionado bien

en algunos de nuestros pueblos y ciudades que no se han hecho que están pendientes todavía sabiendo que hay riesgos y en ese sentido ahí esas son también las cuestiones pendientes hace

el propio director de ura decía a principios de año el señor aiz decía que las actividades que gestiona la cuenca del zadorra

son elementos de gestión eso todavía no se ha producido o que actuaciones pendientes en los ríos batán

esas obras por cuestiones administrativas del ayuntamiento entonces hay elementos que nos llaman la atención y que supongo que serán gestionados coordinados identificados por el gobierno para y como este hay muchas otras cuestiones el otro día hablaban

a cosas que no debieran de producirse porque están pendientes determinadas

que nosotros sí que queremos identificar o sea que aparte de esa evaluación de los daños y de la actuación del gobierno vasco en este momento para las compensaciones para ayudar

ese elemento esencial de cómo valora y cómo planifica el hecho de que hay que mejorar también en el ámbito municipal y foral las actuaciones en relación con estas cuestiones en coordinación desde luego con la actuación

para completar este plan hay que mejorar todavía en ese ámbito muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erkoreka jauna zurea da hitza

habrá podido comprobar que he empezado apelando a la conveniencia de no comenzar el credo por poncio pilato pero es que

entonces bueno su segunda intervención me obliga a dar un poco la mirada atrás y recuperar parte del recitado anterior

el mapa de puntos rojos desde el punto de vista de la meteorología adversa y singularmente desde el punto de vista de las inundaciones

está bastante completo un diseño también de las obras convenientes y necesarias

que arrancó a partir de aquel momento arrancó digamos una dinámica sistemática afrontar las inundaciones a través de medios directos y estructurales que consisten precisamente en la realización de este tipo de obras de infraestructuras en puentes en conducciones en cauces de aguas y de ríos y de medidas indirectas y no estructurales que son las que tienen que ver con la planificación con la prevención y de todo esto que le digo por tanto muchas de ellas se han abordado y a lo largo de la crisis hemos podido constatar efectivamente

a obras e identificaba ura por ejemplo que se llevaron a cabo hace un año hace dos o tres por tanto ese plan de obras está en permanente actualización y en permanente realización algunas corresponden al gobierno vasco

pero esa identificación está razonablemente bien hecha siempre adaptable siempre mejorable y siempre

de actualización por tanto en ese empeño jamás cejaremos y esa es una nunca concluirá porque probablemente la pluviometría en euskadi seguirá siendo importante y seguiremos siendo durante mucho

intentar evitarlas primero a través de ese tipo de infraestructuras de ese tipo de medidas estructurales y directas a partir de ahí

el gobierno vasco tiene ya una cierta trayectoria adoptando habilitando medidas excepcionales que respondan a estas situaciones extraordinarias

voy a citar dos precedentes sin salir del ámbito de las inundaciones si saliéramos del ámbito de las inundaciones podríamos citar otros casos el año dos mil ocho y el año dos mil quince

por parte del gobierno vasco habilitando este tipo de medidas que básicamente incluían ayudas que se gestionaban de diferente manera por distintos departamentos pero siempre inspiradas en dos principios que son fundamentales usted ha hecho referencia al tema de los seguros

han venido inspirando estas ayudas son primero el de complementariedad y segundo el de compatibilidad complementariedad con respecto a la labor que puedan desarrollar a este respecto las compañías de seguros es decir no o no sustituir a las compañías de seguros y al consorcio de compensación de seguros en aquello que les corresponde y que pueden hacer y están llamados y deben hacer y por tanto complementar esa actividad

otras administraciones públicas en ese sentido le puedo decir que

ámbitos de actuación daños en viviendas daños en sectores económicos y daños en vehículos una parte la de vehículos correspondió gestionar el departamento de seguridad

porque todo lo demás estaba cubierto por el consorcio o por las compañías de seguros solo hubo una solicitud por un vehículo que supuso una indemnización de dos mil quinientos euros que sufragó el departamento de seguridad

y ahora en la medida en que la situación y la evaluación de los daños aconseja dotar de una iniciativa parecida se está considerando la posibilidad de hacerlo pero se está esperando también lógicamente a que primero el gobierno central que ha anunciado un paquete de medidas a este respecto diseñe cuál es el alcance y contenido de las suyas

que en el paquete de medidas que tiene previsto incorporar al consejo de ministros en relación con los daños generados por las inundaciones está incluido euskadi

qué es lo que se plantea a ese respecto de qué manera las personas posiblemente damnificadas en euskadi puedan acogerse a ese tipo de ayudas y medidas y a partir de ahí sobre la base de la evaluación de daños hechos y del contraste de información

no se descarta la posibilidad de habilitar un mecanismo similar al que se hizo el año dos mil ocho o el año dos mil quince también en relación con inundaciones con medidas similares o parecidas a las que entonces se plantearon lo cual lógicamente implicará no ya mi departamento sino

erantzun hau eman ziguten el acta de la junta de seguridad del pasado dieciocho de junio recuerda que en materia de investigación de delitos ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente acontecidos en euskadi la competencia corresponderá a la

eman baina ertzainburuak gehitzen zuen desde el mes de junio a la actualidad no ha habido ninguna actuación que suponga una falta de respeto

y cuando la guardia civil hace propaganda de sus actuaciones

cuando se pone medallas el día internacional de los derechos de los animales no sé no me suena a una despedida no me suena a que se estén retirando o que se estén replegando de esta competencia concreta sino que me parece todo lo contrario

en el plan de seguridad pública de euskadi referente a las interpretaciones sesgadas del marco competencial vasco el famoso reposicionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para invadir nichos que no le corresponden es decir una invasión competencial que a mí al menos me preocupa y por eso le preguntaba cuál es la práctica y cuál es la realidad

de que se adecuaran al estricto ámbito de sus competencias o si están haciendo justo lo contrario con esta expansiva que es la yo le estoy preguntando y el quid no es solamente

seprona no es una cuestión de legitimidad competencial sino también qué hace la ertzaintza y si tiene los efectivos los recursos los medios el prestigio que tiene seprona que para mí no lo tiene y para otros colectivos tampoco aquí se adoptó una decisión en dos mil dieciocho para dotar de eficacia a la unidad de medio ambiente de la ertzaintza y hay un montón de puntos

que todo el mundo tiene el acta menos usted a ver le acabo de decir que el acta oficialmente no se ha aprobado y no la tiene todo el mundo lo que se ha reproducido aquí por parte de dos oficiales de la ertzaintza es un acuerdo de esa acta

que sí está consensuado y lo reprodujeron íntegramente no solamente la frase que usted ha reproducido aquí la reprodujeron literalmente entera el acuerdo entero con sus tres apartados donde sí se reconoce una atribución concreta en consonancia

en relación con las actividades que trascienden en el ámbito territorial de la comunidad autónoma yo no conozco

de los medios de la guardia civil no sé si usted se dedica a hacer eso yo no lo hago y por tanto no tengo conocimiento si lo han hecho o no

que lo acordado está consensuado con el departamento de

de interior y que está recogido en el borrador de acta que se aprobará formalmente en la próxima reunión me dice que a partir de ahí de lo que se trata es de prestigiar más los servicios de la ertzaintza vinculados con el medio ambiente porque el seprona según usted tiene un gran prestigio y la ertzaintza

u a otros en fin yo admito que usted tenga unas querencias con tal de

pues prefiera acogerse a cualquier cuerpo policial antes de reconocer el más mínimo

siempre se puede mejorar estamos trabajando en ello por supuesto que yo no digo

cumpla al cien por ciento en todo por supuesto que hay ámbito de mejora en este

y en ello estamos y estamos trabajando todos los frentes y el acuerdo adoptado en la junta de seguridad es un acuerdo que creo yo que es claro y responde claramente al requerimiento de la fiscalía general del estado cuando pide que en el ámbito concreto del medio ambiente deben existir normas claras y precisas ahí en el reparto de competencias entre la ertzaintza y la seprona y el seprona hay normas claras y precisas de eso no hay ninguna duda
esa es la legalidad que hay que respetar por parte de todos eskerrik asko erkoreka jauna

desarrollando las obras del tren de velocidad son de sobra conocidas pero ello no ha sido suficiente para por lo menos hasta ahora que las administraciones vascas

firmes ante la conculcación sistemática de los derechos laborales y de la seguridad y salud en el trabajo que se vienen dando incumplimiento del convenio colectivo

ritmos y sobrecargas de trabajo abusivos y largas cadenas de subcontratación donde es difícil coordinar la prevención de riesgos laborales más de una década de esta obra ha dado incluso para escribir un libro titulado zuloan

un libro que seguro que conoce y que sirve bien para conocer la realidad

y que está basado en el testimonio de muchos trabajadores que se han atrevido a hablar desde la publicación de este libro y a pesar de que muchos de los tramos de las obras

que se describe en este libro se mantienen hasta hoy como nos confirma el sindicato ela que mantiene sus visitas a las obras desde dos mil ocho son diez personas las que han muerto trabajando en las obras del tren de alta velocidad según un informe del sindicato

por las denominadas causas no traumáticas que son las que se relaciona con las cargas abusivas de trabajo

estructura de encofrado el catorce de julio de dos mil ocho en luku por una electrocución en durana once de agosto de dos mil diez por una explosión

por la caída encima de una pieza de gran tonelaje once de julio de dos mil doce en arrasate por atrapamiento por el compresor de hacer la tijera veintiséis de agosto de dos mil trece en bergara

como se ve accidentes en el siglo veintiuno pero por causas que se corresponden con las del siglo pasado y además todas ellas evitables plantilla en su mayoría cerca del ochenta por ciento personas migrantes de las que se aprovecha su situación de vulnerabilidad

en sus países tal y como se recoge expresamente en la estrategia de empleo de su gobierno los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales son uno de los rasgos más extremos y dramáticos de la vigente precariedad estructural sailburu

camiones con itv desfavorable y que transportan el doble de su carga acumulan veinticinco multas de la ertzaintza

y cuarenta demandas en los juzgados vuelvo a insistir señora

ante la precariedad laboral y falta de seguridad que se están dando en las obras del tren de alta velocidad y en las obras del metro de donostia tiene aquí un amplio margen de mejora para demostrar que su gobierno más allá del discurso está dispuesto a comprometerse

ni el metro de donostia ni otras obras públicas que vayan a desarrollarse en el futuro haya que pagarlas también con la salud cuando no con la vida

empleo precario con dinero público y las empresas que están desarrollando las obras en las condiciones de precariedad que denuncian los sindicatos están cobrando dinero público

andrea señora garcia el gobierno nunca mira hacia otro lado

dos mil treinta la estrategia vasca de empleo es una estrategia ambiciosa que nos marca la hoja de ruta que tenemos que seguir el conjunto de las instituciones y desde luego en primera persona asumo la responsabilidad de liderazgo de esa estrategia porque ostento la responsabilidad del departamento

a mi responsabilidad compete trabajamos cada día para que se cumplan las condiciones y sobre todo para orientar al conjunto de la sociedad vasca

de esos objetivos que nos marca la estrategia vasca de empleo dos mil treinta pero como primera reflexión que me merece su interpelación

es importante el impulso al tren de alta velocidad en euskadi y creo que es especialmente relevante que hoy en fechas de debates presupuestarios

sea cuáles son las condiciones laborales en las que se está desempeñando

a mí me correspondió ser portavoz del gobierno vasco un gobierno que hace una década acordó por primera vez con el gobierno de españa la fórmula de encomienda de gestión para estas obras

a pesar de todos los obstáculos algunos incluso de consecuencias trágicas a que se impulsara esta infraestructura que aquella encomienda de gestión fue la que impulsó el despliegue definitivo de la obra en toda gipuzkoa y que también entonces nos correspondiera

por las condiciones de quienes trabajaban allí no solo por su propio trabajo en el tajo sino porque peligraba también su integridad física por la amenaza terrorista

es una inmensa oportunidad por terminar este proyecto lastrado por tantos obstáculos una oportunidad también para ordenar urbanísticamente nuestras capitales

y esa encomienda que llega en el contexto de la aprobación de unos presupuestos generales en españa que además van a ser validados

de la sociedad vasca de los dieciocho diputados que salen de euskadi se sientan en el congreso diecisiete van a dar su voto a favor de los presupuestos generales del estado

alcance y sentido político que creo que debemos destacar en estos tiempos en los que el ruido oculta las decisiones que benefician al conjunto de los vascos pero como dice la señora garcia a nuestro departamento además y como en toda obra pública y privada le compete vigilar

de esas oportunidades de empleo sean de la máxima calidad y seguridad y el pasado mes de mayo esta cámara tuvo la ocasión de debatir como

necesarias y entre ellas no se planteó exactamente ninguna

en origen de la estrategia vasca de empleo dos mil treinta y que se refiere precisamente a las cláusulas sociales

por tanto esa es la primera herramienta de control que tenemos en el departamento la segunda es velar por el cumplimiento escrupuloso de la ley de contratos del sector público que obliga a las empresas que subcontratan obras y servicios el cumplimiento estricto de la legalidad que es precisamente me ha parecido entender una de sus

en su interpelación y puedo compartir que la legalidad puede quedar en ocasiones por debajo de las expectativas la actual normativa laboral ha permitido y permite que las empresas

en perjuicio de las condiciones laborales de las personas trabajadoras por ello creo que para esta encomienda de gestión como para el resto de contrataciones públicas o privadas

en españa que entre otras cosas devuelva a los convenios sectoriales y la negociación colectiva al lugar preferente de regulación de las condiciones laborales una oportunidad también para que todos los grupos que se sientan en esta cámara

tendrán oportunidad de avalar espero que en el plazo más corto posible a tiempo para abordar los trabajos pendientes del tren de alta velocidad y es a partir de ahí donde intervienen también las dos herramientas más efectivas en manos del departamento de trabajo y empleo que son además las primeras que citamos en la estrategia vasca de empleo dos mil treinta que son la inspección de trabajo y la salud y seguridad laboral

desde osalan en este sentido yo le garantizo el compromiso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 que han funcionado con gran eficacia en las grandes construcciones que se han venido desarrollando estos años en euskadi

de la aceleración de estas obras y que luego se han utilizado en otras ahí participan las administraciones las empresas y los agentes sociales

ante cuatro buenas noticias uno la garantía de unos presupuestos generales del estado alineados con los de euskadi y con las necesidades de los vascos y avalados por la mayoría de los vascos la garantía de que vamos a culminar la mayor infraestructura en nuestro país las oportunidades de empleo que esta

y el compromiso de mi departamento que está comprometido en velar por las condiciones de las personas trabajadoras de la mano del conjunto de los agentes sociales

existentzia bukatzen bada de sus palabras quiero entender que no ocurre como ocurrió el otro día en la comisión cuando nos informaron los sindicalistas

negó el diagnóstico negó la realidad quiero entender que en ese compromiso firme

parten del hecho de que efectivamente hay mucho que mejorar y que existe una situación denunciada por los sindicatos que está ahí no creo que la consejera de trabajo y empleo piense que todos los sindicatos mienten y hoy hablamos de las condiciones laborales

del impacto medioambiental de estas obras ni vamos a hablar del derroche económico que ellos suponen vamos a hablar del tema de las condiciones laborales que creo que además se ha hablado

pero bueno además de ese compromiso firme que nos ha expresado nos hubiera gustado haber oído también unas medidas

es mala creo que habrá posibilidades insisto si hay voluntad política para acordar

kostuak merkatzea etekin ekonomikoa handitzeko y la tercera es establecer mecanismos de control eficaces

en nuestro ámbito sino que además hay que establecer mecanismos para que se controle que se cumplen que se cumplen las cláusulas sociales la contratación las normas de prevención para ello le quiero recordar que en el marco de la estrategia de empleo

se compromete a reforzar la inspección laboral aumentando los ratios de personas inspectoras de trabajo para llegar a las medidas a las medias vigentes en europa

he visto que también se habla de reforzar la inspección de trabajo amaitzeko eta lehen esan dizudan bezala obra publikoetan kalitatezko

nosotros no negamos la realidad en el gobierno vasco

por lo que he podido observar también a la hora de preparar esta interpelación que me presentaba usted hoy he podido también hacer un seguimiento

que su grupo ha dirigido al departamento de transportes y que este ha dado cumplida respuesta hoy me ha preguntado a mí y yo he respondido desde el ámbito de mis responsabilidades pero a mí lo que me consta también de las respuestas

ante la existencia de determinadas denuncias ha habido después acuerdos negociados para solucionar esos problemas con los propios sindicatos

de transportes a la hora de hacer estas contrataciones las exigencias son altas pero dicho esto yo creo que el cauce a través del cual se tienen que canalizar las denuncias y quien tiene que ser la herramienta y es la herramienta porque así se marca por la ley es la inspección de trabajo usted señalaba tres medidas como conclusión de su interpelación hoy aquí

bueno yo le he señalado un camino que puede funcionar que son las comisiones de obras públicas donde se sientan todas las partes puede ser esa una de las soluciones desde luego la mesa de diálogo social aunque a ustedes no les parezca importante a mí me parece que es un órgano central para las políticas públicas y sobre todo para establecer políticas vinculadas con las regulaciones laborales y que en definitiva afectan a la salud laboral y a la calidad del empleo

esperamos que dentro de poco alumbremos un acuerdo en la mesa de diálogo social que se está llevando a cabo en madrid que nos permita tener una legislación laboral más garantista y por último usted hablaba de mecanismos de control eficaces y de la inspección de trabajo bueno saben ustedes señores del grupo de bildu pero el conjunto de la cámara que este departamento tanto desde que estoy yo al frente como

lleva aumentando la plantilla de inspectores de trabajo y de subinspectores de manera permanente pero también saben ustedes y no vayamos a hacernos trampas en el solitario

que lance el ministerio de trabajo y que luego quieran ser cubiertas por los propios inspectores que han obtenido por lo tanto nosotros como comunidad autónoma estamos haciendo los deberes estamos proveyendo las plazas las estamos dotando presupuestariamente estamos creando también la inspección para el tema de la igualdad y de la salud laboral por lo tanto estamos

pero que sepa usted que este es un tema que ocupa y preocupa en la mesa de diálogo social a los agentes sociales y económicos que se sientan en ella y que preocupa y ocupa al gobierno vasco señalaba usted que precisamente en el consejo de osalan cuando se ha aprobado esta misma semana la estrategia para los próximos cinco años

el acuerdo y una reclamación compartida que nosotros como gobierno compartimos y vamos a seguir creando más plazas de inspectores de trabajo no lo dude en los próximos

porque así lo hemos señalado también en los presupuestos y yo

la nueva estrategia de salud laboral veintiuno veintiséis que tendremos ocasión de analizarla en profundidad en el próximo año a mí me parece que ha sido un intenso trabajo en el que han participado el conjunto de los departamentos del gobierno pero también en el consejo de osalan

y el próximo martes les anuncio que lo informaré en el consejo de gobierno y cuando se inicie el nuevo año dos mil veintidós quiero hacer un acto divulgativo de esta estrategia porque me parece importante que empecemos a pensar en la salud laboral de una manera como hace veinte años se pensó con la seguridad en el tráfico nadie daba importancia al cinturón de seguridad y a tantas y tantas cosas que han evitado muertes

contemple la seguridad laboral como algo cotidiano en su vida y

en el día a día de la ciudadanía y por lo tanto queremos divulgar esta estrategia y queremos compartirla con ustedes cómo no y queremos incluir en ella que la hemos incluido

de los trabajadores que también tiene que ver con muchas patologías los riesgos psicosociales que son muchos bueno en fin yo creo que es una estrategia a la altura de los tiempos
que tenemos que afrontar y seguiremos trabajando eskerrik asko mendia andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa

muchas gracias señora presidenta señorías

bien le presento una interpelación en el día de hoy

se me ocurría que podía ser un buen día para hacer un poco balance de lo que ha venido haciendo la función y el trabajo sobre todo de su departamento en lo que ha sido lo que llevamos de legislatura

por elaborar un poco hacer digamos un mapa de cuestiones que se han hecho que no se han hecho y que me gustaría discutir con usted

le hago un repaso y luego me podrá seguramente puntualizar

bien en su comparecencia inicial ante la comisión correspondiente de instituciones de este parlamento expuso usted lo que iba a ser las líneas generales

hizo hincapié en una serie de cuestiones se mencionó mucho la expresión modernización de la administración se habló de la digitalización de la estructura administrativa se habló también de la necesidad de tener en cuenta a las personas que las personas son lo más importante las personas son siempre lo más importante pero en la administración específicamente

a la labor que hacen las personas al servicio de las administraciones públicas y también hizo referencia a una serie de cuestiones las leyes que tenía pensado tramitar

como proyectos de ley y luego también hizo una curiosa referencia a lo que es la actividad contenciosa hizo ahí un alegato en defensa

que me resultó un poco curiosa pero bueno y luego finalmente

pues el euskera la euskaldunización de su departamento de los funcionarios de la sociedad ese proceso de transformación de la sociedad en el que su partido

vamos a hacer un pequeño repaso una breve síntesis primer punto digitalización en digitalización tenemos tres empresas al menos que son

que se supone que son las responsables de hacer el proceso o por lo menos que son responsables de implementar hacer compras de materiales de ordenadores formación etcétera y que hombre registraré más preguntas sobre esta cuestión pero mirando un poco los presupuestos y lo que ha sido también la ejecución

respecto de lo que usted nos comentó al principio de la legislatura me dirá hombre señor gordillo todavía tengo tres años hombre pero es que llevamos también mucho tiempo esperando porque el programa que usted nos presentó señora consejera era exactamente el mismo programa que nos presentó

y es el que se viene repitiendo por parte de los consejeros con responsabilidades en administraciones públicas o como llama ahora su gobierno a este departamento autogobierno gobernanza etcétera y es año tras año

han empezado su tramitación y se han quedado por el camino en cuanto a este proceso de digitalización me preocupa bastante preocupa especialmente en el repaso

que a treinta de diciembre pues hombre las inversiones reales de su departamento están solo ejecutadas al treinta y ocho por ciento imagino que en diciembre pues como suele pasar el último mes del año es el mes que se hace todo lo que no se ha hecho en el año anterior

que parezca que estamos ejecutando aunque sobre esto hablaremos en la siguiente interpelación

pasa siempre con el capítulo de inversiones ya lo sabemos un problema de ahí la siguiente interpelación por eso no me detendré aquí siguiente punto las personas

nos ha presentado dos proyectos de ley en realidad era una misma cosa pero se desgajó como todo el mundo sabe en esta cámara la ley de cuerpos y escalas

acelerar y buscar alguna solución al gravísimo problema que sufre nuestra administración el resto de las españolas también pero es que aquí en euskadi es particularmente grave en algunos

según reconoció el propio gobierno vasco en algún recurso ante el tribunal constitucional más o menos en la mitad

y se desgajó una pena que ahí no pudiéramos llegar a un acuerdo porque yo solo les pedí para apoyar esta ley que introdujeran

los grupos que apoyan al gobierno entiendo que con su conocimiento consejera y aquí quiero compartir mi tristeza con usted no fui capaz de persuadirlos

todavía a ver cómo se va desarrollando pero no parece que esto vaya a ser una no parece que podamos encontrar una solución

y es que todavía no se ha hecho un diagnóstico de por qué yo en todas las comparecencias que ha tenido usted en la comisión sino en todas en casi todas le he preguntado a propósito de esta situación es decir por qué tenemos ese nivel por qué tenemos ese grandísimo nivel de interinidad en las administraciones públicas si no se conoce la causa cualquier solución

se vaya llenando en cuanto a las medidas

que todavía está en tramitación también aunque ya se presentaron las enmiendas por parte de todos los grupos

esta ley para presentar una serie de medidas modernizadoras para darle ideas simplemente porque yo creo que la modernización de las administraciones como usted misma ha reconocido varias veces es un proceso constante yo le he dado varias ideas pero una vez más no me he encontrado con receptividad por parte del gobierno en su caso los grupos que lo apoyan no son cosas que me invente yo es decir no hay más que acceder

y ahí hay una serie de materiales y de estudios que especifican qué medidas tienen que adoptar las administraciones modernas para ser realmente modernas cercanas a la ciudadanía etcétera

sobre lo que tiene que ser el liderazgo en materia de función pública también es un libro bastante amplio está en la página web

yo de ahí me he permitido extraerles unas cuantas medidas primero un estatuto de los directivos del sector público vasco por ejemplo oiga que no sea todo esto el cómo se ha entendido la administración digital es el problema lo de nombrar siempre a dedo a los altos cargos y a los directivos

entonces hombre yo creo que sería conveniente que estableciéramos unos procesos abiertos totalmente abiertos y que las personas pudieran espontáneamente presentar sus candidaturas incluso a los altos cargos

he propuesto entre otras cuestiones que antes del nombramiento de los altos cargos quitando los miembros lógicamente del consejo de gobierno

una audiencia digamos en la comisión correspondiente oiga y que cada seleccionado

y las muchas virtudes que adornan a su persona y que le hacen merecedora de ser designado alto cargo del gobierno vasco tampoco tampoco me dirá hombre señor gordillo eso no lo hace ningún gobierno y tal bueno oiga es que

y esto va a llegar antes o después o tendría que llegar entonces yo creo que aquí podríamos asumir nosotros un poquito de liderazgo siempre que se habla pero tampoco les propuse también un régimen jurídico también básico

y sobre todo un verdadero sistema de evaluación externo de las políticas públicas un sistema de evaluación externo de políticas públicas tampoco tampoco tuve suerte en eso dice no señor gordillo si en la ley del sector público se habla autoevaluación

pues hombre yo creo que las políticas públicas tienen que ser evaluadas por parte

sí que le he visto una cierta actividad en el tema contencioso no conozco muchos casos pero bueno sí que ha invertido tiempo gente de su departamento afín y tal en este libro un bestseller en el ámbito de la administración pública la erosión silenciosa que es como se llama

que supuestamente tiene el gobierno vasco frente a esos ataques al autogobierno que siempre

digamos que pergeña y que diseñan los gobiernos centrales independientemente de su color político

pero tampoco me parece que aporta demasiado la mejor defensa del autogobierno

consiste en incrementar la colaboración entre las administraciones públicas evitar solapamientos y hacer énfasis en el reclutamiento de los funcionarios y el personal al servicio de las actuaciones públicas seleccionar a los mejores

esto es lo que me preocupa y por eso la interpelo hoy cuáles son los propósitos suyos sobre todo

me va a permitir que realicé mi propio resumen

ya avancé en mi primera comparecencia ante esta cámara

es modernizar y mejorar los servicios públicos de la mano de la digitalización de la administración colocábamos a las personas como eje central y destino de todas nuestras políticas públicas para ello es necesario seguir trabajando en una administración moderna y eficiente

una administración transparente comprometida con la participación ciudadana y el buen gobierno

apunta al avance en la consecución de una administración más cercana sencilla y eficiente contempla la aprobación de la ley del sector público sí así como el rediseño del modelo de relación de relación perdón de la administración con la ciudadanía

para simplificar como usted bien sabe el proyecto de ley del sector público fue depositado para su debate y aprobación ante esta cámara hace ya unos meses y esperaremos que sea aprobado a principios del próximo año se trata de una ley vital

la que mejor se adecue a los retos cambiantes que tenemos por delante pero asimismo

este martes el consejo de gobierno aprobó ardatz el plan estratégico de gobernanza e innovación pública y gobierna digital dos mil treinta

y la calidad del servicio público al tiempo que propone avances en materia de gobierno digital ardatz viene a dar respuesta a dos

por un lado el compromiso de la puesta en marcha de la estrategia vasca digital

y por otro lado el de la elaboración de un plan estratégico de gobernanza e innovación pública se trata del instrumento transversal

cabe señalar así a modo de pincelada iniciativas en los ámbitos de atención ciudadana

servicios digitales interoperabilidad gobernanza del dato inteligencia artificial sistemas de identificación rendición de cuentas o el gobierno abierto

recientemente además también aprobamos el plan estratégico

dos mil veintiuno dos mil veinticuatro que abarca a todo el sector público y establece un nuevo modelo de gestión de las nuevas tecnologías más eficiente coordinado ágil y cercano en el servicio público que prestamos a la ciudadanía como he dicho en alguna otra ocasión

así lo atestigua en los últimos dieciséis meses ha habido veinticuatro millónes de visitas a la sede electrónica un incremento de más del sesenta y cuatro por ciento

ha recibido más de trescientos ochenta y dos millónes de visitas

asimismo el incremento del uso del noventa por ciento en nire karpeta mi carpeta que roza los siete millónes de visitas y seguimos poniendo en marcha nuevas iniciativas como esta misma semana habilitando la posibilidad de realizar pagos

en relación al gobierno abierto parte fundamental de una administración moderna en lo que va de legislatura se ha elaborado el segundo plan interinstitucional para avanzar en gobierno abierto en euskadi es un plan cocreado con la ciudadanía

con la colaboración de la sociedad civil y de forma coordinada entre los tres niveles institucionales de euskadi por su parte

el personal empleado público cómo no resulta clave lo menciona usted en su iniciativa cuando apela a su ordenación y reestructuración no obstante obvia la reciente aprobación o ha obviado luego lo ha mencionado de una ley promovida por este departamento

ordenación reestructuración y adaptación del personal al plan bolonia la referida ley de cuerpos y escalas partiendo de esa base

efectivamente en el ámbito de la función pública como son actualizar las relaciones de puestos de trabajo aprobar la nueva oferta de empleo público

y reducir las elevadas tasas de interinidad así como ir afrontando el relevo generacional de una manera acompasada

facilitamos a nuestras trabajadoras y trabajadores además su aprendizaje y desarrollo profesional

en áreas que van desde la igualdad el euskera la protección de datos de carácter personal o incluso la ciberseguridad finalmente en relación con el autogobierno de euskadi dice usted que no se entienden los procesos de recentralización por parte del estado ni cómo afectan al bienestar de la ciudadanía aunque menciona y lo ha enseñado la publicación la erosión silenciosa

compendio de informes jurídicos rigurosos y objetivos que dan cuenta de esa recentralización

una lectura sosegada y sin prejuicios evidencia dicha realidad con casos concretos y reales este gobierno no renuncia a sus valores

la cooperación o la bilateralidad así como tampoco renunciamos a lo que legalmente está reconocido en nuestro estatuto en dos vertientes por un lado la defensa del autogobierno reconocido mediante la reacción política y jurídica

y en defensa de las normas y actuaciones de las instituciones vascas cuando se pone en tela de juicio su constitucionalidad y por otro lado reclamar el autogobierno pendiente de transferir hasta culminar lo pactado y refrendado en el estatuto de gernika en este sentido hemos dado pasos

incluida la gestión de instituciones penitenciarias aunque al mismo tiempo somos testigos en primera línea

es materializar los compromisos ya no solo reconocidos en una ley orgánica sino contemplados en un cronograma propuesto por el propio gobierno del estado no obstante

y la bilateralidad como instrumentos que resultan mucho más constructivos que el enfrentamiento la desconfianza y el conflicto todo ello en aras al desarrollo pleno de nuestro autogobierno

mayor cercanía en la toma de decisiones basada en un mejor conocimiento de las necesidades de la ciudadanía jaurlaritzaren asmoei buruz galdetzen zenuen zure interpelazioan

gracias señora presidenta señora consejera yo soy muy paciente tanto que le hago preguntas a su departamento le presento interpelaciones para que

estoy dispuesto a firmar incluso un acuerdo en esta cámara

del desarrollo futuro de la ley de protección de personas denunciantes por ejemplo que por cierto se cumple el plazo de la transposición de la directiva sin que

modernización de la administración pero vamos a ver si las leyes que nos ha traído son todos los textos de dos mil quince en el mejor de los casos con informes ya caducados en muchos casos del sector público por favor que en medio tuvimos las otras leyes nacionales que modificaron enteramente las administraciones públicas

que es que no aporta nada es que ya se lo he dicho la ley del sector público vasco es que no aporta nada para eso hubiera sido mejor un texto refundido un texto refundido es que no aporta nada se puede hacer un compendio

hace usted un compendio de las normativas vigentes ordenaditas y se las da a los funcionarios y a los empleados públicos lo del plan bolonia hombre

yo tengo valor pero usted me supera vamos el plan bolonia como usted lo llama el punto fundamental es precisamente el trabajo por competencias y la evaluación por competencias de eso no se dice nada en esa ley que yo sepa pero bueno la importancia de las personas ostras genial la importancia de las personas y tiene al cincuenta por ciento de las

en una situación de inseguridad absoluta hombre pues no sé yo digitalización

a su equipo de meter en la ley del sector público vasco era precisamente la

hace falta en algunos casos hasta tres certificados distintos digitales para hacer según qué trámites administrativos online claro luego claro cuando venimos los grupos de la oposición haciendo propuestas de este tipo siempre lo que les preocupa son los plazos ustedes no quieren plazos usted solo el gobierno

hombre irán todos los lunes y se irán los viernes pero avanzar avanzar en algunas cosas no lo veo

eso que ha dicho de mayor autogobierno es mayor bienestar

mayor cercanía recupero la frase del valor mayor cercanía pero vamos a ver y por qué una vez centralizamos algunas competencias del gobierno vasco las diputaciones

pero el gobierno vasco hace todo lo contrario si en la ley de aportaciones lo que hemos visto es lo contrario es aumentar los coeficientes en favor del gobierno vasco pues hombre no me diga que no bueno luego voy con usted

pero bueno luego lo comentaremos también entonces hombre yo creo de verdad señora consejera que es que es un año en el que

entiendo que se la pide también a la ciudadanía pero lo cierto es que no hemos visto absolutamente

de cuándo si claro si para ir ahora a hacer cualquier gestión hay que pedir hora evidentemente por las normativas con cierta antelación y tal pues lógicamente la gente se organiza sus vidas e intenta en la medida de lo posible acceder y

que hay que hacer en persona yo por eso de verdad señora garamendi le animo a que sea ambiciosa y que

le proponemos para mejorar y sobre todo para modernizar las administraciones yo estoy de acuerdo con usted que es un proceso continuo evidentemente pero es que de las medidas modernizadoras que no son mías eh no son de luis gordillo son

son las que los países más desarrollados están intentando y están implementando de hecho

por eso yo creo señora consejera que el primer año no hemos hecho nada mal quedan todavía tres años y seré paciente como usted dice pero la seguiré controlando políticamente porque yo creo

señor gordillo nada más lejos de la realidad espero convencerle

quisiera incorporar mayor detalle sobre algunos aspectos que se mencionan en su interpelación en relación a la mención que realiza sobre el grado de ejecución de las partidas presupuestarias debo señalarle que como usted mismo puede observar en el último informe publicado este departamento ha autorizado gastos que alcanzan el noventa y siete coma uno por ciento del total de su presupuesto

se han autorizado gastos que cubren el noventa y siete coma siete por ciento de su presupuesto

ascienden al noventa y nueve coma nueve por ciento del presupuesto todo ello en cuanto a la objetiva realidad que aportan los datos aunque personalmente no me gusta fijarme únicamente en el aspecto cuantitativo y siempre trato de profundizar en el aspecto cualitativo

modernizar la administración requiere implantar cambios profundos en el ordenamiento jurídico cambios que nos doten de nuevas herramientas y nos permitan diseñar e implementar planes de actuación usted señor gordillo de manera crítica la ejecución presupuestaria y sin embargo resta importancia a los diversos proyectos de ley que estamos tramitando desde el liderazgo de este departamento llevamos demasiado tiempo con los proyectos de regulación sobre la organización y funcionamiento del sector público vasco

el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora hasta cinco cinco proyectos de ley tiene este departamento ahora mismo en trámite en esta cámara así a las ya mencionadas hay que añadir el proyecto de ley de empleo público efectivamente y el proyecto de ley de recurso de casación civil necesitamos esas normas institucionales y además continuaremos trabajando en su desarrollo y nuevas regulaciones de cara al futuro esperamos contar con el apoyo y altura de miras de su grupo en este camino la mano como siempre está tendida tanto a su grupo como al resto de la oposición si hablamos de reformar la función pública ese reto requiere de herramientas legales

y por tanto la seguridad jurídica se impone este gobierno ya estaba aquí con la ley de cuerpos y escalas sí

quién iba a pensar hace quince años que nuestras competencias estatutarias exclusivas en nuestra función pública

en este sentido los cambios constitucionales exprés en la crisis económica gestionada por el pp acabaron en mecanismos tales como la limitación de la creación de empleo público

que inciden en el mismo este es uno de tantos ejemplos de centralización que afectan a nuestra ciudadanía atender a nuestro autogobierno

y evitar su recorte y la revisión retrograda de nuestras capacidades de decisión y de poder hacer una política pública vasca le recuerdo

eso supondría perpetuar el incumplimiento de una ley orgánica si usted no acaba de ver en qué estarían afectando esos procesos al bienestar de la ciudadanía vasca quizás ese problema sea que desde luego no compartimos la misma visión sobre el autogobierno y la descentralización del estado contempladas en nuestro estatuto

muchas gracias señora presidenta señor azpiazu ya estoy con usted la interpelación que le plantee la otra vez y la que por cierto no se pudo no pudo tener lugar porque no pudo usted venir y me alegro de que ya esté mejor

algún par de semanas pero lo cierto es que cuando uno analiza el presupuesto y analiza pues las distintas variables etcétera la verdad es que es de la máxima actualidad todos los días y creo desgraciadamente que no va a perder

y yo creo que ni en los próximos años hay un problema serio de ejecución de los presupuestos

me puede hacer como ha hecho antes su compañera disfrazar un poco la cifra importante porque la cifra importante son las inversiones ah que yo he ejecutado casi el cien el noventa y tantos por cien claro que puede decir eso pero si las inversiones

que son realmente digamos las políticas de transformación de cambio de inversión en la sociedad no se llevan a cabo pues de poco sirve decir que

el dinero en hacer las compras necesarias pues para que la ciudadanía tenga unos servicios básicos evidentemente pero es que

que usted me lo podrá decir seguro que lo tiene en su intervención

administraciones es que la vasca es la que más ejecuta y tal habrá que verlo pero sobre todo a mí lo que me parece es que a la hora de hacer un presupuesto si ya partimos

es que es usted demasiado generoso con las cifras claro usted quería pintar un cuadro macroeconómico pues de una transformación de la economía justo solo en euskadi el resto de españa no ni el resto de europa tampoco pero euskadi iba a ser vamos extraordinario

para dibujar un presupuesto que digamos encajara dentro de lo que se pretende siempre que se presenta un presupuesto que es el mejor del mundo el más expansivo

todos los presupuestos que presenta el gobierno es así pero luego nos encontramos con lo de siempre que luego hay que ir corrigiendo últimamente ya claro como le insistimos tanto le insisto yo tanto pues últimamente ya corrigiendo ya sobre la marcha el otro día corrigió aquí el cuadro macroeconómico nos dijo oye que he corregido el cuadro macroeconómico y repitió

claro claro y ha corregido el presupuesto no o sea

es en el que se basa el presupuesto cambio el cuadro macroeconómico es decir los indicadores de crecimiento de inflación de consumo etcétera lo cambio pero no cambio el presupuesto

porque da igual es que da igual tener es que usted lo sabe además da igual tener presupuesto que no tener presupuesto es que da absolutamente igual si luego si se prorroga el presupuesto y ya tienes disposiciones de gasto para los sueldos para las competencias básicas etcétera para sanidad para

es que son siempre las mismas partidas es que lo hemos visto en las más de mil quinientos

eso es trabajo fino para que luego no digan que si es trabajo de brocha gorda ostras mil quinientos enmiendas no se hacen en dos días eh pues que ahí lo hemos podido ver es que son las mismas enmiendas de siempre y lo que hemos hecho ha sido

ha sido reducir las partidas en las que se observa una inejecución sistemática

pues mire en el año dos mil veinte ya tenemos los datos un remanente generado de quinientos cuarenta y dos millónes en el año dos mil diecinueve es cierto que

ejemplo es el único año dos mil diecinueve eh y todos sabemos por qué por el tema de la pandemia año dos mil dieciocho un remanente generado de trescientos setenta y tres millónes año dos mil diecisiete otros remanente generado de cuatrocientos cuarenta millónes año dos mil dieciséis este un poquito

comparando con los remanentes de otros años pues efectivamente casi casi parece entonces claro y luego cuando se les dice oiga es que tenemos ahí un remanente acumulado muy importante por qué no lo devolvemos al presupuesto no joe señor gordillo es que si ahora meto el remanente claro me baja el haber y entonces me bajan los y entonces claro a la hora de calcular el déficit en el que puedo incurrir y oiga pues yo no le digo que lo haga de una vez si yo le dije

hagámoslo poco a poco porque claro cómo es posible cómo es posible que es que tengamos tantísima dificultad para ejecutar las partidas y para gastar el dinero público entonces si el cuadro macroeconómico da igual

sabemos que no se van a ejecutar si es que ya lo sabemos hoy que no se van a ejecutar mil seiscientos millónes claro no se pone

de partido y de grupo en este caso relativo al tema de los proyectos europeos

es una situación con el tema de los fondos europeos que no es soportable pero en el caso de los fondos europeos qué hemos hecho pues en lugar de hacer como el gobierno de españa que ha metido las partidas dentro del presupuesto

meteremos en el bien claro y así no se notará que otra vez

es que es lo que pasa siempre cómo es posible que el gobierno vasco en el año de la pandemia gastara doscientos cincuenta y ocho millónes de euros menos que el año anterior vamos a ver es que el dinero público es de quién paga los impuestos es que esto es una cosa que parece que no llegamos aquí a asumir el dinero

y el gobierno es un mero fidecomisario es decir el gobierno simplemente es el que lo administra

si su gobierno el gobierno de ya iremos viendo ya iremos viendo que no le gustan los plazos ya iremos viendo si son incapaces de gastar el dinero oiga

vaya recaudando menos vaya estableciendo algún tipo de prima progresivamente siempre me dice no no es que eso señor gordillo cómo se nota que no conoce la estructura

cuanto antes aprueben ciertos incentivos fiscales en tema de política de vivienda con lo cual oiga cuando se quiere por supuesto que el gobierno vasco tiene herramientas y muchas no solamente de persuasión para poder revisar un poco la presión fiscal

ha dejado de gastar novecientos noventa y cuatro millónes me voy solamente al apartado de inversiones solo al apartado de inversiones en dos mil veinte se dejaron sin ejecutar casi cien millónes noventa y cinco millónes en inversiones en dos mil diecinueve ciento treinta y dos

claro ante este panorama qué quiere usted que yo le diga señor azpiazu es que

de ejecución porque vuelvo a insistir si no somos capaces de ejecutar para qué ponemos esas cantidades en un presupuesto que sabemos que no se va a cumplir para qué

porque es la técnica de cómo se hacen los presupuestos en euskadi cómo hacemos los presupuestos en euskadi muy sencillo primero dibujamos un panorama económico que va a ser impresionante pero vamos esto impresionante vamos a crecer más que nadie consumo disparado pero más que nadie

los indicadores le están diciendo lo contrario señor azpiazu le pregunto oiga el petróleo no eso no va a afectar oiga el precio de la energía no eso no va a afectar oiga el precio de las materias primas no eso no va a afectar bueno de repente con ese crecimiento

pues entonces dibujamos unos ingresos que son altísimos que son altísimos y entonces a partir de ahí luego podemos dibujar que se va a recaudar mucho y que por tanto

y entonces ya tenemos que los presupuestos son los más sociales los más tal y los mejores

entonces qué haces pues vas corrigiendo poquito a poco sin que se note mucho un día nueva economía un poquito menos

y claro cómo hacemos el ajuste pues el ajuste lo hacemos claro de repente dicen ahora tenemos que cuadrar

de remanente y no incurrir como diría aquel y cómo desgraciadamente sufren muchas familias en números rojos

cuando se hacen unos presupuestos yo creo que lo que hay que hacer sobre todo es

y por eso el problema fundamental del presupuesto es que no es ni la deuda ni tal ni siquiera la inflación que está desbocada que por cierto claro eso le vendrá bien porque recaudará un poco más pero es que

por qué somos incapaces de ejecutar sobre todo el capítulo de inversiones qué nos pasa

llevamos cerca de dos años viviendo una situación que ojalá no hubiéramos tenido ni que soñar

en octubre del diecinueve usted no estaba en este parlamento aún

europa y tuve la oportunidad de hacer un repaso de los años de salida de la anterior crisis

y del impacto en el diseño de los presupuestos que esa crisis había tenido en aquel momento dije que nos encontrábamos en tiempos de tender puentes de acordar entre diferentes

fíjese que caprichosa es la vida porque hoy estamos en la misma situación aunque ustedes se resistan pero vuelvo a referirme a la cuestión

comenzamos la anterior legislatura celebrando los vientos de cola que empujaban el crecimiento de la economía vasca desde que la recuperación se iniciase tímidamente en el año dos mil catorce un favorable contexto exterior la reducción de los precios del petróleo

altas tasas de crecimiento que se mantuvieron en el entorno al tres por ciento durante el periodo dos mil quince dos mil dieciocho

por una contención salarial muy superior al de las economías europeas conseguimos salir con dificultad de la gran crisis de deuda a escala global y hubimos de vigilar que nuestro desapalancamiento fuera efectivo pero también equilibrado para permitir el crecimiento

reconfigurándolo en una parte considerable tuvimos que afrontar aquella situación sobre todo a través de los gastos de personal que suponen más del cuarenta por ciento del presupuesto y también de la inversión decidimos priorizar la protección de las personas y los servicios públicos fundamentales en especial la salud es una prioridad

fíjese nuestro objetivo fue consolidar un crecimiento potencial del dos por ciento que se compusiera de al menos un punto de productividad y dejara otro punto para el empleo el alto crecimiento económico nos permitió recuperar el nivel de pib previo a la crisis en el año dos mil dieciséis pero en el caso del presupuesto esa recuperación

aún dos años más los efectos de crecimiento en la recaudación

este gobierno consiguió mantener el superávit presupuestario desde el diecisiete y nuestra gestión económico financiera nos ha permitido comenzar a rediseñar

estoy seguro de que usted conoce los rating que tiene este gobierno y que avalan la solvencia de nuestras emisiones de deuda y esa gestión económico financiera ha sido la que ha garantizado

y sólida al estallido de la crisis generada por la covid el hecho de contar con remanentes y suficiente liquidez nos permitió

activando medidas de apoyo a sectores afectados a empresas a autónomos pero también aumentando lo que ha sido necesario los recursos destinados a la salud a la educación y a las políticas sociales tras la declaración de emergencia el consejo de gobierno adoptó el diecisiete de marzo del veinte

mediante la creación de un programa covid dotado con cerca de novecientos millónes de euros esta crisis ha revelado por desgracia el acierto de una gestión reciente de las cuentas públicas que favoreció la consolidación fiscal y mantuvo una actitud de prudencia respecto a eventuales modificaciones adicionales a la baja de los ingresos fiscales

a su gestión económico financiera me refiero a la del gobierno no a la suya evidentemente

y así hemos conseguido hemos considerado que los sectores de actividad que más han sufrido los perjuicios económicos derivados de la pandemia tienen que recibir nuestro apoyo

en consecuencia hemos activado innumerables líneas de ayudas tales como apoyo financiero a pymes y autónomos aplazamientos de reembolsos de ayudas reintegrables

y relanzamiento de empresas en crisis varias líneas de ayudas extraordinarias a autónomos

ayudas en forma de reducción de costes financieros de carencias en prestamos formalizados ayudas al sector de la restauración a la hostelería a los profesionales a la cultura

a las sociedades anónimas laborales y a las cooperativas ayudas a las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo

etcétera dicho esto afrontamos el dos mil veintidós con una clara apuesta por la inversión pública

un cincuenta por ciento más que este ejercicio por qué porque entendemos que es el momento de reactivar nuestra economía y generar empleo

usted sabe que en esto coincidimos y el gobierno va a hacer todos los esfuerzos para ejecutar

la ejecución del presupuesto consolidado del gobierno vasco fue del noventa y ocho coma nueve por ciento usted ya sabía que se lo iba a decir pues se lo digo efectivamente y

y le voy a dar un dato además que a usted le va a gustar mucho más sabe cuál fue la ejecución de la comunidad de madrid

noventa y dos por ciento eso el global cuánto habrá sido la inversión pregúntele

la ejecución del año veinte en los capítulos seis siete ocho el gobierno vasco fue del ochenta y nueve por ciento del presupuesto final

yo creo que son datos que efectivamente son mejorables pero que son datos realmente importantes para su tranquilidad los ingresos contemplados en el presupuesto de dos mil veintidós

a que no se vean afectadas por las revisiones de crecimiento económico que pudieran darse

la revisión la realicé cuando dije que la iba a realizar una vez conocido el dato del tercer trimestre

y no evidentemente cuando usted me lo estaba pidiendo porque entonces no había datos relevantes estadísticos para que lo hiciera y la revisión apuntaba a una bajada efectivamente del cinco coma seis por ciento en relación

pero por otra parte la revisión del año veintidós nos lleva a que el crecimiento de la economía sea un cero coma tres por ciento mayor del que pensábamos anteriormente porque hay una parte del crecimiento

también como usted ha avanzado pero cómo tenía que criticar que esto no cuadraba con los presupuestos que hemos presentado

crece en el nueve coma tres por ciento y esto lo que sí nos garantiza es que los ingresos

van a dar seguramente sobradamente capacidad suficiente para cumplir con todas las políticas y todos los compromisos en materia de gasto público

no hay manera pero yo creo que se quedará tranquilo con este crecimiento de la economía en del año dos mil dos en lo referente a que el presupuesto

alcanzable en toda su dimensión en materia de empleo la revisión de las previsiones apenas trae cambio respecto a las de septiembre el número de personas según el nuevo escenario encontrar empleo lo hicieron trece mil trescientos noventa en el año veintiuno

en el veintidós la evolución favorable del empleo tendrá también su reflejo en la tasa de paro que se situará este año en el diez por ciento

el año próximo los nuevos datos de crecimiento estimado por el eustat para el tercer trimestre han resultado como es conocido ya sensiblemente inferiores al previsto

de las previsiones de crecimiento de la economía española que han pasado del seis coma dos al dos coma dos y esto como usted bien sabe y por la relación que tiene euskadi con la economía española

realmente importante otra parte de la modelación

de producción dado que la oferta no está siendo capaz de responder en tiempo

esto es especialmente evidente en sectores como el de la automoción que se están viendo obligados a parar ante la falta de componentes y la alta demanda de bienes existe y es cuestión de tiempo que la oferta se ajuste a la fuerte demanda

no de una debilidad necesariamente del tejido productivo o dicho en otras palabras que parte del pib que no se va a generar este año

gracias señora presidenta bueno pues señor azpiazu evidentemente la verdad es que yo no conozco a nadie que me dé tanto la razón y que sin embargo no me haga caso absolutamente en nada o sea es que

por qué tenemos estos problemas de ejecución concretamente en inversiones y me otra vez es que me habla de que la sanidad es un servicio pues evidentemente que la sanidad es un servicio o sea básicamente lo que extraigo de su intervención es

gestionamos fenomenal y si van mal es culpa de elementos extraños exógenos o exteriores vamos a ver yo creo que es muy mala técnica muy mala técnica presupuestaria constante el ir acumulando un excedente presupuestario de esa forma

acumulado que solo es la administración general de euskadi es que si luego empezamos a sumar lanbide doscientos setenta millónes

es que lo que yo no entiendo es qué interés tiene el gobierno vasco en estar durmiendo encima de una bolsa de dinero mientras hay problemas reales en la sociedad y mientras es que hay problemas reales con los empresarios es que hay problemas reales con el sector productivo y esto usted lo tiene que saber señor

las ayudas que vienen del ministerio cuánto hemos devuelto ciento y pico millónes si mal no recuerdo es que se ha devuelto dinero qué problema ha habido ahí lo hemos evaluado no oiga y qué pasa ahí es que claro las ayudas de elkargi es que luego

para darte dinero te exige que tengas dinero y claro como tú no tienes dinero por eso he venido

oiga yo creo que este dinero que tenemos yo no digo que no haya un fondo de contingencia evidentemente usted sabe perfectamente

que es la bolsa que luego utilizan para negociar unas cuantas partidas con los grupos el código famoso código noventa y nueve de los presupuestos otros gastos ese famoso otros gastos

efectivamente pero es que no entiendo esa obsesión con acumular ese dinero porque luego encima lo pretende

a costa de los impuestos y del esfuerzo de la ciudadanía se presenta como un éxito no no

no vamos no quepo en mí no lo entiendo la verdad es que sencillamente no lo entiendo el problema con los datos

por el gran parón mundial de toda la actividad incluso también la económica esas cifras que estamos conociendo ahora como usted lo sabe

o va a haber unas cifras ahora a corto plazo de crecimiento muy altas pero la que nos viene encima es complicada esos famosos cuellos de botella que cada vez son más preocupantes de los que usted habla en la cadena de suministro que tienen que ver con el transporte marítimo mundial

y luego la inflación porque a usted a lo mejor para cuadrar su planilla y tal la inflación

cuál es el siguiente punto usted y yo lo sabemos el siguiente punto va a ser la renegociación de los convenios colectivos lógicamente al alza entonces claro si tú tienes una inflación del cinco coma cinco seis por ciento los siguientes son los convenios colectivos otro

yo el futuro desgraciadamente no lo veo como lo ve usted ojalá fuera

hacer es utilizar precisamente los fondos que tenemos para

al sector productivo para salir de la situación en la que estamos y prepararlos de verdad para salir de esta situación en la que estamos y lo único y lo último que le digo me gustaría de verdad que me diera alguna razón

qué viene nuestra incapacidad para ejecutar se lo concreto el capítulo de inversiones dentro del presupuesto porque hombre los sueldos y tal todo eso sabemos que son cuestiones automáticas pero las inversiones me puede decir mire señor gordillo es que las licitaciones son muy complicadas y luego la gente me las recurre bueno

por la que somos incapaces de ejecutar las inversiones y cuál es la razón por la cual de los mil seiscientos millónes que usted mil seiscientos cinco millónes

el año que viene por estas fechas que espero que estemos todos aquí el año que viene por estas fechas le volveré a decir

y por qué no hemos pasado del cincuenta por ciento de ejecución

señor gordillo no es el lugar adecuado para cruzar apuestas pero lo del cincuenta por ciento se la cogería de inversión mire esperaba no tener que bucear en una cascada de datos porque lo que usted y este

desde luego y así lo creo firmemente y por eso lo digo gestiona económica y rigurosamente y responsablemente las cuentas económicas bien solvente y coherente con nuestras necesidades para desarrollar las políticas públicas pero le voy a describir el escenario también con algún detalle los remanentes de tesorería

pero una vez deducidos los remanentes afectados y los derechos de dudoso cobro el remanente disponible

este incremento en los remanentes al finalizar el pasado ejercicio se debió a nuestro superávit presupuestario en dos mil veinte que fue de quinientos cuarenta y uno millónes de euros

no vino provocado por una baja de la ejecución de gasto sino por los mayores ingresos derivados de nuestro endeudamiento recurrimos a nuestro máximo permitido

a la situación de pandemia dicho de otra manera el gobierno vasco incurrió en más endeudamiento de forma consciente premeditada y planificada para contar con recursos suficientes

de mayor tensión porque pensábamos que más valía prevenir que curar

y ayudas a sectores más afectados por la pandemia por lo que el total de remanentes disponibles a fecha de hoy asciende a los seiscientos sesenta millónes de euros aprovechamos señor gordillo la suspensión por parte de la unión europea de las reglas de estabilidad y la situación de los mercados financieros

y políticamente adecuadas a un coste mínimo lo cual entendemos que es doblemente positivo

y dar respuesta a un mundo endeudado y una globalización en repliegue

a la transición demográfica a la transición ecológica y la amenaza de la desigualdad económica y de género

debemos recuperarnos de las enormes heridas que está generando la pandemia que ha revelado la vulnerabilidad de la vida y el riesgo que puede llegar a suponer para la dignidad

es que las prioridades y los objetivos deben cambiar en alguna medida hace falta una respuesta comunitaria en un momento en el que redescubrimos que el avance de un país descansa en las personas

en que desplieguen toda su capacidad de trabajo y creación y sobre todo en que destaquen por su actitud de cooperación eskerrik asko eskerrik asko

esaten den bezala tampoco podemos aceptar jugar con algunas cartas marcadas

egiten jarraituko dugu y hay que tener en cuenta efectivamente que mediante el régimen de conciertos educativos se regula el sostenimiento con fondos públicos

hitzez hitz corresponde a las comunidades autónomas dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos

el concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto al régimen económico

prórroga y extinción del mismo número de unidades escolares concertadas rendición de cuentas planes de actuación y adopción de medidas en función de los resultados académicos obtenidos y demás condiciones con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos

dice el concierto económico tendrá una duración

y de cuatro años en el resto de los casos y estos preceptos normativos también tienen su reflejo

alegia por todo ello el concierto educativo se configura como el instrumento jurídico

no universitaria en régimen de gratuidad un instrumento de naturaleza convencional

que ya están definidos y el centro se compromete por su parte a impartir gratuitamente las enseñanzas correspondientes la extinción del concierto tiene lugar

como es el caso sin perjuicio de los supuestos de renovación

la asignación se realiza en función de modelos económicos por unidad escolar aula y el nivel educativo fijados en la ley de presupuestos y esto no tiene más vuelta y se derivan en definitiva de lo que hay que pagar por el módulo de profesores

y por lo que se le llama también la reposición de inversiones reales y están definidas así en estos cuatro bloques y en esos cuatro bloques hay que ayudar o financiar

y en respuesta a la pregunta no es ninguna novedad y así lo hemos trasladado en respuesta por escrito a diversas iniciativas planteadas por su grupo que el periodo de concertación actual

modificada mediante la orden de veintisiete de mayo de dos mil veinte que regula las condiciones de suscripción y renovación de conciertos educativos para los cursos escolares comprendidos entre dos mil dieciséis y diecisiete y dos mil veintiuno veintidós finaliza en el curso dos mil veintiuno dos mil veintidós indarrean dagoen

le voy a hacer la pregunta de otra manera gauza guzti horietan zuk komentatu gauza gehienetan ados gaude logiko

zailtzen duelako voy a hacer la propuesta de una forma muy concreta

se lo digo con la propuesta de que queremos trabajar consensos importantes en la ponencia consensos importantes en la futura ley medidas importantes para garantizar

en términos de igualdad y de equidad el sistema educativo de euskadi por tanto como muestra también y esa es la propuesta que queremos hacer en el día

lógicamente a través de la propuesta de moción que vamos a presentar es que el departamento de educación prorrogue los conciertos educativos uno o dos cursos lo necesario para desarrollar el acuerdo de la ponencia tener la nueva ley y que en base a la nueva ley se desarrollen

esto lo que es es un acuerdo bilateral esto quiere decir que necesitamos de un acuerdo entre las dos partes

y también digo que hay una serie de partidas hay una serie de cuestiones que nos están trasladando los diferentes centros de educación concertados

adecuación desde el año dos mil ocho dos mil nueve revisión que quizá pues también habría que analizar es decir

que hay que analizar hay una serie de cuestiones que por ejemplo hay profesores personal docente que está ayudando profesor profesionales docentes del ámbito de la educación especial por ejemplo que no están financiados en su totalidad que también están suponiendo una serie

con lo cual yo lo único que le puedo decir es que acepto con agrado lo que es su propuesta lo que le digo es que la tendremos en cuenta desde

dos el analizar si la otra parte también entiende que es posible o no es posible desde el punto de vista económico pero lo más importante

tiene que ser compatible con el acuerdo que se vaya a adoptar o con el desarrollo legislativo o normativo que vayamos a tener en los dos próximos años totalmente de acuerdo porque no es únicamente lo que vayamos a acordar aquí en el parlamento

señores consejeros mire mi pregunta tiene que ver con que a principios de año ets

la demolición del edificio de la estación de zarautz por un importe de nueve millónes a construcciones amenabar y la pregunta

gracias señora presidenta señora larrea la estación de zarautz cuenta en la actualidad con la mayor demanda de viajeros

al oeste de donostia san sebastián y se prevé que esta demanda experimente

de la variante ferroviaria de donostia san sebastián que conlleva como bien sabe la apertura de tres nuevas estaciones mejorando la accesibilidad de las zonas de benta berri y centro la concha y si bien el trazado del ferrocarril en zarautz se ha ido permeabilizando durante los últimos tiempos con actuaciones como la supresión del paso a nivel y la construcción del paso inferior de santa clara

requiere de la adopción de nuevas medidas que mejoren entre otras cuestiones la conexión entre el norte y el sur del municipio en particular

no se podían acometer desde un punto de vista técnico manteniendo

y esta es la razón fundamental por la que se ha planteado la construcción de una nueva eskerrik asko arriola jauna larrea andrea zurea da

derribar el edificio de la estación de tren en vez de adecuarlo a los tiempos actuales un edificio acorde al entorno histórico del pueblo y del tránsito del siglo diecinueve al siglo veinte una de las épocas doradas

nadie entiende su próxima demolición es inminente salvo el gobierno del pnv del ayuntamiento y el gobierno vasco ha tenido que ser la mayor organización no gubernamental de españa en defensa del patrimonio

de españa no lo ve usted así lo dice también el director del museo vasco del ferrocarril que es una de las personas con mayores

a nivel nacional y europeo sobre el tema en todo caso es lamentable que quienes tienen el deber y la obligación de proteger nuestro patrimonio y nuestra historia

monumental y natural incluyendo la estación de zarautz en la lista roja de patrimonio en peligro mire nueve millónes de euros se van a gastar ustedes para la demolición de un edificio que forma parte

eviten esta sin razón y replanteen el proyecto es más importante el soterramiento de las vías a su paso por la villa que el derribo de esta estación gracias

responde a la necesidad de ofrecer una infraestructura ferroviaria eficiente y accesible a la ciudadanía algo

edificio que por cierto solo conserva de manera puntual algunos elementos de la fachada original tampoco es un edificio objeto de protección

del centro de patrimonio cultural vasco ni en el listado de inmuebles de patrimonio histórico artístico y arqueológico de gipuzkoa y como ya le he señalado

como por ejemplo que los usuarios en sentido zumaia deban de cruzar la vía por un paso a nivel para acceder

además el planeamiento municipal contempla la principal conexión peatonal y ciclista entre el norte de la ciudad y el futuro desarrollo del ámbito de salberdin

mediante el desarrollo de un gran paso inferior en la ubicación del actual edificio de la estación un paso que únicamente es posible ubicar en este entorno

con la estación actual en su lugar se va a construir una nueva estación completamente integrada en el entorno y con estándares de calidad de este siglo sin olvidar los referidos a accesibilidad perspectiva de género y seguridad ferroviaria estamos hablando de un proyecto que tiene un presupuesto de

financiado conjuntamente por el departamento de transportes

gracias al convenio suscrito entre ambas instituciones y en el que nuestro departamento aportará el sesenta y seis coma siete por ciento del presupuesto y el ayuntamiento de zarautz el treinta y tres coma tres por ciento restante

sin ningún voto en contra en resumen

persigue mejorar la conexión segura y accesible entre los andenes

al que le afectará el incremento de demanda previsto por la línea bilbao donostia

la variante ferroviaria del topo señora larrea sea un poco seria me critica una actuación que mejora la accesibilidad

que cuesta ocho coma uno millónes de euros y que se financia conjuntamente entre el ayuntamiento y el departamento y me habla usted del soterramiento

en qué quedamos eskerrik asko arriola jauna

esta no es una cuestión de imposición tal y como usted plantea sino de que el ordenamiento territorial de euskadi integre al igual que lo hacen ya

una figura específica relativa a proyectos de interés general en este caso medioambiental que cuente

que quiere conseguir o preservar entendemos que esta figura ágil pero también garantista es necesaria mientras en paralelo nuestro ordenamiento territorial se adapta a los nuevos e importantes retos medioambientales a

con herramientas como el plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos cuya elaboración se va a poner en marcha el próximo año en el seno del gobierno vasco

sostenibilidad y medio ambiente en coordinación con nuestro departamento eskerrik asko arriola jauna fernandez de betoño jauna zurea da hitza

y que por cierto funciona con normalidad y sin polémica además sabe

a residir no en un departamento concreto ni en una consejera concreta sino en el consejo de gobierno y su tramitación va a ser participativa y garantista

de aprobación con diferentes pasos en los que se requiere información de intervención municipal

del país vasco que la ley de ordenación del territorio se ha modificado a través de la de administración ambiental efectivamente y se ha hecho así

contando con el acuerdo de los dos departamentos afectados no hay ninguna imposición pero es que además que una ley modifique otra ley es práctica habitual del parlamentarismo la próxima ley de vivienda estatal modificará con toda probabilidad la ley

nuestra ley de vivienda que ustedes votaron a favor modificó la ley del suelo y las leyes de presupuestos suelen cambiar en muchas ocasiones leyes sectoriales

también dicen ustedes que los proyectos de interés público superior son un atentado contra la autoridad municipal

diferencia de criterio que tienen a la hora de tratar este mismo tema en navarra y en euskadi usted ponía un ejemplo de navarra pero comprenderá que llama poderosamente la atención

gestionó durante cuatro años la cartera de desarrollo rural medio ambiente y administración local

y no adoptaron ningún tipo de medida para frenar esta supuesta pérdida de autonomía municipal

ha asegurado recientemente que no estamos ante una figura que erosione la autonomía municipal

un respeto a la autonomía municipal y la conozco bien porque

conozco el planeamiento incorporado y el hecho de que existe una serie de infraestructuras de interés general como las ferroviarias o las carreteras por citar algunas

y sé la importancia que tiene para los alcaldes el que haya unas reglas claras que ofrezcan seguridad jurídica

pero también creo que los municipios van a poder ser muy exigentes con los proyectos y defender que estén bien fundamentados y van a poder contar con las herramientas que para ello les da esta ley

no es el de una confederación de reinos autistas de taifas sino el de una comunidad que convive de forma responsable

señora consejera el mal llamado labi técnico y digo mal porque

empezando por su coordinador por personas que tenían no

muy técnico ha sido sustituido por un miniórgano político que encabeza usted en la toma de decisiones en relación

cuando al principio de la pandemia no se quiso contar con el consejo asesor de enfermedades infecciosas un órgano específico creado ad hoc para situaciones como la que estamos viviendo estamos en una situación

de contagios esta es una tónica general y mientras tanto este gobierno

de prescindir de la opinión de los expertos de los que saben en un momento en el que señora consejera las aulas están confinadas los alumnos en casa los padres asumiendo responsabilidades que no les corresponden el departamento de salud cambiando las directrices y dando directrices contrarias

como le decía la contraria la atención primaria

de personal con un problema estructural que arrastramos desde antes de la pandemia y ahora sin duda se ha visto agravado con una red de rastreo que no da abasto y que incluso deriva su labor a la atención primaria que como le digo no sabe no contesta

esta mañana usted va a seguir permitiéndose el lujo de seguir no contando con la opinión

señora garrido creo de verdad que debería revisar o sus fuentes de información o la veracidad

que el consejo asesor de enfermedades infecciosas emergentes se creara para situaciones como la que estamos viviendo verá que está equivocada

la a que efectivamente y se lo dije el pasado lunes en la comisión de salud no veo el labi técnico no carece de personas expertas en enfermedades infecciosas respiratorias

ni falta de expertos en salud pública ni falta de

somos cómo no conocedores del ámbito sanitario

que no sé qué sentido tiene que comparezca periódicamente ante la comisión de salud para responder a sus preguntas si luego ignora completamente las respuestas ya le dije el pasado lunes y lo repito hoy que el nuevo labi técnico no carece de personas expertas en enfermedades infecciosas respiratorias

de expertos en microbiología ni de expertos en salud pública

porque el nuevo labi técnico responde a necesidades diferentes a las del año pasado y se lo dije

y cómo se contagia sabemos cómo prevenirlo y tenemos herramientas para ello pero el labi técnico debe analizar también el efecto

mire señora consejera sí me gustaría empezar con una aclaración cuando usted comparece en la comisión de salud se limita

tenemos ocasión de visualizar y de analizar en los boletines epidemiológicos correspondientes y no contesta

qué pasa con las personas discapacidad grado tres no institucionalizadas que usted no dice nunca nada ni en la comisión ni en esta tribuna ni cuando habla públicamente y esta parlamentaria se lo pregunta reiteradamente y creo que es una cuestión que ahora está preocupando

mire también tiene dos alternativas dejarse asesorar o no dejarse asesorar y está claro que usted ha tomado la opción segunda no dejarse asesorar por aquellos que saben pero no lo digo yo lo dicen las voces autorizadas

porque usted ha decidido a lo largo de toda esta pandemia rodearse de su guardia de corps y no hacer caso

de los que realmente saben señora consejera y por eso ustedes dan titubeos ustedes dicen una cosa y al día siguiente la contraria ustedes

denostaban el pasaporte covid y luego fueron sus máximos defensores como les ha pasado también con la mascarilla

cuando la señora murga nos decía que las mascarillas no valían para nada otra cuestión la red de rastreo mientras otras comunidades autónomas

usted lo va a solicitar porque ayudaría a cortar la transmisibilidad del virus o va a hacer como con los expertos orillar a los expertos y aquí guiarse por sus fobias sus desconfianzas y sus prejuicios

sagardui andrea zurea da hitza señora garrido de verdad que no me escucha

vuelve a preguntar lo mismo y la respuesta es la misma lógicamente y además

sitúese en el momento y no se quede en el inicio de la pandemia por supuesto que vuelvo a repetir mascarillas obligatorias mire no le voy a citar

de los que usted dice que no hay josé luis quintas viceconsejero de salud sí es un cargo público pero antes de serlo ha sido y es un reconocido técnico y gestor en salud

directora de salud pública que antes de serlo ya era una reconocida experta de la oms por cierto nuestra voz en la comisión de salud pública del sistema nacional de salud técnico cuya capacidad y criterio nadie discute

josé antonio iribarren especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de nuestro hospital itziar especialista en enfermedades infecciosas en el ámbito de la pediatría

desde su aparición en la legislatura anterior la lucha contra la pandemia con conocimientos además amplios en epidemiología y en medicina de familia rosa pérez directora general de osakidetza que antes de serlo

ola como responsable médico del hospital de basurto y el resto

personas que aportan otras visiones a la hora de evaluar el efecto de que las medidas de prevención tienen sobre la ciudadanía no está su voz autorizada lo siento pero no descalifique a estas personas no descalifique porque parece ser

voz autorizada es esa que usted parece conocer y no otra eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako

buenos días de nuevo presidenta consejera señorías desde el inicio de esta pandemia he sido crítica con la forma en la que el gobierno vasco ha manejado la información y comunicación acerca de la crisis sanitaria de las medidas adoptadas de las razones que motivaron su aplicación sobre la vacunación las diferentes vacunas y la inmunidad asociada a una y otra y muchas otras cuestiones de las que hemos ido hablando repetidamente esta misma semana hemos sido testigos de la confusión

en casi todo de las quejas de los hosteleros convertidos en vigilantes con conversaciones cruzadas sobre la validez de la medida sobre la vigencia en el tiempo del certificado en cuestión en este contexto cobra especial importancia esa dosis de refuerzo que se inoculará a mayores de cuarenta también saber qué grado de inmunidad aporta

cuáles son los planes del gobierno vasco y los plazos con los que trabaja

como ustedes bien saben porque lo hemos compartido en diferentes ocasiones los planes y los plazos de proceso de vacunación en euskadi

por la disponibilidad de vacunas algo que ya no es una preocupación y por los criterios que se establecen en la comisión de salud pública de la estrategia de vacunación contra la covid hemeretzi

en función de la evolución de la pandemia de la investigación científica y de la disponibilidad de vacunas y precisamente fue ayer mismo cuando la comisión de salud pública fijó
las prioridades y criterios para avanzar en la administración de la dosis de recuerdo a nuevos colectivos eskerrik asko

señora sagardui quien más quien menos todos somos conscientes de que las vacunas contra la covid diecinueve no son vacunas al uso han sido desarrolladas de forma acelerada

sobre los efectos secundarios que pudieran provocar sobre la vigencia de la inmunidad que generan y también sobre el número de dosis necesarias para que esta sea la mayor posible son dudas que no han sido resueltas algo que no me cabe duda alguna ha desanimado a muchas personas a inyectarse aquella vacuna que la administración considerase adecuada o aquella de la que dispusiera en cada momento concreto la información no ha sido clara y precisa en este como en otros asuntos

y que también es responsabilidad de la administración la vacunación es un ejercicio voluntario como lo reconoce nuestro marco legal y hasta donde yo sé sigue siéndolo también en pandemia en consecuencia no parece justo a limitar el movimiento y las relaciones sociales de estas personas a las que además se señala como culpables de la sexta ola cuando no lo son y además como un riesgo para la ciudadanía

es vacunación obligatoria lo que está usted haciendo saltándose todos los pasos a los que obliga a nuestro marco legal y hace escasos minutos nos ha anunciado además su intención de ampliar los lugares a los que se impedirá acceder a personas sin certificado covid lo ha dicho el lehendakari en su anterior intervención hasta su viceconsejero de salud el señor quintas ha aportado pruebas en este sentido al precisar en una entrevista que se le hizo en radio euskadi que

cívica y no por una cuestión de salud cuando usted misma ha defendido justo lo contrario

sino para tenerlos controlados porque hay divergencia de opiniones aquí y aquí en esta misma cámara acaban de decirnos que pretenden extender la imposición del certificado covid

también lo harán con los estadios de fútbol por ejemplo el miércoles pasado un titular resumía el momento que vivimos pase covid desde hoy para casi todo el próximo titular será pase covid para todo

la medida que están tomando como una medida de control y ya no queda duda de que es una vacunación obligatoria a base de violación de los derechos de colectivos concretos

por ejemplo una vigencia de un año desde la inoculación de la última dosis la unión europea defiende nueve meses eso es lo que defiende la unión europea en francia tiene una validez de siete meses cuál es el criterio científico que avala ese plazo de un año aquí en el país vasco cuál es la evidencia científica para que esto sea así es usted consciente de la desconfianza e inseguridad que genera este baile de cifras

en vox estamos muy lejos de su línea de limitación de movimientos del uso del certificado covid por vulnerar derechos fundamentales y la arbitrariedad no es buena consejera

es usted consciente del discurso que ha hecho es usted consciente del alegato que ha hecho porque a mí no me ha quedado claro o no me quiere quedar claro es usted

sí escúchese a sí misma y usted sí que le ha hecho flaco favor

a esta sociedad y a esta pandemia de verdad hágaselo mirar escúchese a sí misma y lo verá porque es que

si hasta ahora usted no se ha dado cuenta y ahí es una discusión

y menos mal que la sociedad en euskadi lo tiene muy muy claro cosa que usted debiera de aprender

ni de derechos fundamentales que debe usted saber también más que el tribunal superior de justicia y que el supremo por supuesto euskadi va a seguir

con los criterios establecidos ayer por la comisión de salud pública no porque lo hemos hecho siempre sino porque desde el gobierno vasco somos quienes hemos reiterado

la necesidad de acelerar en lo posible tanto la vacunación

iniciado como las dosis de recuerdo para la población todas las vacunas tienen una efectividad medida en tiempo y todas

todos los años compartimos además la decisión de administrar esta tercera dosis a quienes se inyectaron las dos dosis de astrazeneca independientemente porque originariamente se preveía una inmunidad alta pero con un mayor tiempo de duración es lo que ha ocurrido con pfizer o moderna que todavía tienen unos periodos

entre dosis y hacia la tercera dosis en estos momentos tenemos vacunadas con las dosis de refuerzo al setenta y tres por ciento de las personas mayores de sesenta años y tenemos previsión de finalizarlo en breve

lo han entendido mejor que usted a partir de este momento podemos pasar al grupo de cincuenta a cincuenta y nueve precisamente cuando se cumplan los seis meses preceptivos de espera desde que se les administró la segunda dosis establecido

zurea da hitza gracias señora presidenta buenas tardes a todas y todos